se me sienta ahí mesedez plenoa hastera doa que va a empezar el pleno

en la presentación que esta iniciativa quisiera referirme fundamentalmente a tres aspectos

y aprobación por el gobierno de una exposición de esta naturaleza en segundo lugar el contenido concreto del proyecto de ley

al procedimiento seguido para su aprobación es decir a su tramitación en lectura única directamente

como todos ustedes bien conocen el artículo diez de la ley nueve barra dos mil quince de veintitrés de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciséis determina el límite máximo del endeudamiento

de euskadi dicha limitación del endeudamiento durante el ejercicio dos mil dieciséis se estableció de conformidad con las previsiones de recaudación por tributos concertados para ese año aprobadas por el consejo vasco de finanzas

del año dos mil quince y con los acuerdos alcanzados en materia también de estabilidad entre la administración del estado y la administración de la comunidad autónoma de euskadi

como objetivo del déficit para el ejercicio dos mil dieciséis el cero coma tres por ciento de la comunidad autónoma estas previsiones eran coherentes con la senda de consolidación fiscal fijada por el consejo de la unión europea

se modificó en agosto del dos mil dieciséis revisando

la revisión de la senda de consolidación fiscal fijada por el consejo de la unión europea ha posibilitado a su vez una revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria déficit público y deuda pública de la administración de la comunidad autónoma de euskadi

decisión del consejo de la unión europea por otro lado las previsiones de cierre de la declaración por tributos concertados

aprobadas por el consejo vasco de finanzas en sesión de catorce de octubre de este año han estimado una reducción

en consecuencia la pre liquidación de las aportaciones de las diputaciones forales

incluida en la ley dos barra dos mil siete de veintisiete de marzo ha estimado una cifra inferior en algo más de trescientos veinticuatro millónes de euros a los considerados en los ingresos presupuestados el año dos mil dieciséis

previstos por las aportaciones de las diputaciones forales como la ampliación

entre la comunidad autónoma de euskadi y la administración del estado aconsejan y justifican aumentar

en un importe razonable para mantener el necesario equilibrio presupuestario entre los estados de ingresos y gastos aprobados en la ley nueve barra dos mil quince de veintitrés de diciembre

para el año actual deben ser coherentes con el nuevo escenario descrito hori dela eta egoki eta komenigarritzat jo da

egin gabe esta ampliación del saldo del endeudamiento a largo plazo sin embargo deberá sujetarse a los nuevos objetivos de

de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciséis de manera que también se garantice la estabilidad presupuestaria

esta se limita a la modificación del artículo diez de la ley nueve barra dos mil quince de veintitrés de diciembre de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año dos mil dieciséis ampliando en trescientos veinticuatro coma cuatro millónes de euros

con objeto de hacer frente a la idónea financiación de los programas de gasto para este ejercicio

se añade un nuevo apartado cuatro a dicho artículo diez donde se condiciona el importe máximo del endeudamiento formalizado durante el ejercicio dos mil dieciséis al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados para dicho ejercicio al amparo del concierto económico en resumen

de intentar lograr el necesario equilibrio presupuestario para la ejecución

de manera que la financiación necesaria para dicha ejecución se realice con cargo a las operaciones de endeudamiento para lo cual se prevé la ampliación del límite

bidez en efecto tanto el objeto como el contenido

a través del referido trámite parlamentario dado que se dicta en las circunstancias de carácter extraordinario se circunscribe a los límites materiales

de su aprobación y entrada en vigor antes de que finalice el vigente ejercicio presupuestario dado que la formalización

antes del treinta y uno de diciembre de este año en tal sentido el presente proyecto de ley de naturaleza presupuestaria se limita a modificar

dos mil dieciséis además debe resaltarse la simplicidad en su enunciación y contenido un único artículo a la naturaleza

otras razones que aconsejan su tramitación por lectura única tales como las circunstancias de carácter extraordinario

de las aportaciones de las diputaciones forales y la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma de euskadi

de este ejercicio presupuestario así como la urgente necesidad de poner en marcha en el más breve plazo posible las operaciones

batean por último también quisiera señalar que la aprobación de esta iniciativa no persigue dar un cheque en blanco al gobierno para aliviar la ejecución presupuestaria no se trata de incrementar

y obligado control del parlamento sino por el contrario se trata de dotar de la mayor capacidad de financiación posible a la administración de la comunidad autónoma de euskadi con el fin de afrontar los compromisos de gasto previstos en los presupuestos

las principales partidas y políticas públicas nada más

muchas gracias señora presidenta nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley porque evidentemente responde al acuerdo de estabilidad firmado con el gobierno de españa y cumple los requisitos

se establecían no obstante sí queremos decir que es una mala noticia para los vascos tener que traer como primer proyecto de ley una autorización para emitir más deuda porque no se han alcanzado

por el consejo vasco de finanzas para este ejercicio y aquí lo que quiero decir es que llevamos ya dos años y el gobierno vasco debería de replantearse

fallan y fallan por mucho el año pasado en el dos mil quince por más de cuatrocientos millónes de euros que se saldó la ejecución presupuestaria inejecutando como nos dijo el señor consejero anterior

la inversión bien este año nosotros aprobando esta ley esperemos o esperamos que esas inejecuciones no sufran como sufrieron el año pasado las inversiones o las ayudas a los autónomos

eso se refleja en el menor crecimiento y en la propia menor recaudación de las diputaciones forales vía impuestos

me va a entender perfectamente y es que proyectos de ley como estos hemos visto varios en este parlamento este es el primero que viene sin anexo y cuando digo que viene sin anexo digo que viene

afecta o no afecta y por lo tanto nosotros vamos a votar a favor también porque entendemos que esta autorización es una previsión

pero también esperamos que no se tenga que llevar al límite la autorización del deuda que se emite y me explico el consejo

desde entonces es evidente que ha habido reformas fiscales que han afectado y que han incrementado esa recaudación

y por lo tanto eso sin contar con que a lo mejor nos toca hoy el gordo de la lotería verdad y se incrementaría

pero por lo tanto entendemos que esta autorización de gasto que vamos a dar hoy a este gobierno se traduzca primero

y le digo esto porque usted sabe como yo que en el presupuesto

asciende a mil ciento treinta y uno millónes de euros y con esta autorización la emisión de deuda

y por lo tanto estaríamos hablando de que estaríamos emitiendo deuda para pagar gasto corriente y eso sería todavía peor noticia que la primera

alcanzado las previsiones previstas de recaudación la segunda sería que estamos pagando gasto corriente con la emisión de deuda y usted sabe que además de que en fin de que legalmente tiene sus complejidades es una mala noticia para un gobierno

vivir simplemente pues es una mala noticia porque antes o después

yo no me voy a extender mucho en esta primera intervención vamos a aprobar este presupuesto no es cierto que nos dé más capacidad de financiación porque teóricamente con el proyecto de ley que ustedes nos han traído el presupuesto sigue siendo el mismo alcanza la misma cantidad

de hecho no han variado el artículo veintisiete que es la previsión de ingresos

mantienen en el proyecto de ley de presupuestos la misma previsión de ingresos se incrementa aquí se autoriza o el parlamento vamos a autorizar

que este año sí se hagan las inversiones previstas en el presupuesto de este año y de momento nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías hace un año los socialistas

que hoy se pretende modificar hace un año los socialistas tuvimos aquel posicionamiento como en los dos ejercicios presupuestarios anteriores porque teníamos el compromiso con la ciudadanía

con recursos económicos suficientes aquella aprobación presupuestaria no era tanto un respaldo al gobierno como el cumplimiento del compromiso que los socialistas teníamos con la agenda social de euskadi porque planteábamos soluciones a los problemas aunque estuviéramos

hace tres años los socialistas tomamos dos decisiones estratégicas en la pasada legislatura

en políticas públicas esenciales y segundo presentaba iniciativa de una reforma fiscal

que permitió disponer de más ingresos y posibilitó establecer los créditos presupuestarios necesarios para la recuperación económica la creación de empleo y aumentar también la cohesión social unas propuestas que ya habían dejado para el dos mil dieciséis un rastro

los socialistas trabajamos los tres últimos presupuestos cumpliendo nuestro compromiso de plantear como digo soluciones a problemas y soluciones a las necesidades de la ciudadanía hoy ante la modificación de la ley de presupuestos que nos propone el gobierno

y respaldaremos esta modificación que nos va a permitir cerrar el ejercicio presupuestario dos mil dieciséis como bien decía el señor damborenea sin recortes ni en políticas sociales

y atendiendo los derechos subjetivos que hemos aprobado en este parlamento volvemos por tanto los socialistas a avalar por coherencia una decisión que adoptamos hace un año la de sacar adelante los compromisos adquiridos con la sociedad vasca a través de las partidas económicas que aprobamos en los presupuestos de dos mil dieciséis y que considerábamos

que eran esenciales para lograr el objetivo de una euskadi más solidaria más competitiva más sostenible la modificación legal que hoy nos trae aquí el gobierno lo ha explicado el consejero pretende ampliar el límite máximo de endeudamiento

de la revisión de la senda de consolidación fiscal que ha realizado el consejo

en agosto y es conocida la posición de los socialistas vascos en lo que respecta a la deuda pública y al endeudamiento

tiempo sonaban ecos en esta cámara mensajes apocalípticos en torno a nuestro endeudamiento esos mensajes se confrontaban con los que desde el otro extremo reclamaban saltarse todas las reglas que se debían cumplir por parte de las cuentas públicas en esta europa que nos guste más o nos guste menos

estando mucho ruido había entonces cuando los socialistas decíamos lo que décimos hoy que las cosas en euskadi iban progresando adecuadamente aunque con dificultades y que debía imperar la mesura y la prudencia teniendo en cuenta la coyuntura económica y social vasca

en nuestra praxis política no íbamos a traspasar el gobierno de patxi lópez en plena crisis económica

tuvo que echar mano del recurso extraordinario del endeudamiento porque se imposibilitaba una reforma fiscal consensuada en esta cámara que hacía imposible obtener los recursos financieros

aquella legislatura y desde entonces hasta hoy hemos mantenido el mismo discurso y la misma actitud los socialistas porque a nosotros las cifras que nos preocupan

o las inversiones estratégicas que no se pueden realizar porque no nos llega el dinero y que sin embargo son cruciales para el crecimiento económico de euskadi por eso además de comprometernos expresamente con el cumplimiento de las reglas económicas europeas

estamos comprometidos con el crecimiento económico y con el empleo con el mantenimiento de las políticas sociales y con la mejora de los servicios públicos ese es el compromiso de los socialistas vascos también hoy y también para el futuro y por eso hemos suscrito el acuerdo que garantiza la gobernabilidad de euskadi

esta modificación legal presupuestaria es un acto de coherencia para los socialistas coherente con lo que hicimos en el gobierno hace dos legislaturas coherente con los presupuestos que aprobamos durante tres años y coherente con el acuerdo que hemos suscrito hace un mes nos preocupa nos preocupa y mucho la reducción de ingresos en las previsiones de cierre

nos preocupa tanto por su cuantía como por el hecho en sí porque si no se hubiera dado esta relajación del objetivo de déficit estaríamos en una situación presupuestaria

las claves de lo que ha ocurrido para establecer soluciones y medidas eficaces con el fin de que las previsiones de recaudación por tributos concertados se ajusten lo más posible a la realidad porque lamentablemente el recurso del endeudamiento adicional que hoy estamos avalando no va a servir para hacer nuevas cosas a las ya previstas inicialmente en los presupuestos no va a servir para atender nuevas

va a servir para dar cumplimiento a lo comprometido en los presupuestos generales de euskadi para este año dos mil dieciséis para en definitiva culminar los proyectos que ya habíamos aprobado y dijimos hace un año que estos presupuestos de dos mil dieciséis

de haber gobernado los aprobamos porque a través de un pacto presupuestario se incorporaban nuestras propuestas propuestas que fueron herramientas en favor del empleo

en favor de varios centenares de familias que ya pueden ejercer su derecho subjetivo a la vivienda en más de mil trescientos familias a las que no se les ha cortado la luz o el gas por impago

proyectos culturales y asociativos que han sido importantes no solo para la reactivación económica que sí sino también para la cohesión social en euskadi y por esa coherencia
los socialistas vamos a apoyar la modificación legal que ha propuesto el gobierno nada más muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea gorospe andrea zurea da hitza

segundo pleno ordinario me toca subir aquí

representación de la coalición elkarrekin podemos para defender el derecho de la ciudadanía vasca

seguir endeudándose cuando no sea necesario hace algunos años se nos decía que la crisis había llegado porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades porque según algunos expertos y algunas expertas pues no sabíamos sino endeudarnos para seguir con nuestra utópicas vidas de

bajo la que podríamos recostarnos tranquilamente a la noche que no fuera de un techo de mil estrellas hoy en día sin embargo

tenemos que seguir endeudándonos pero tenemos que seguir endeudándonos ya no para ir una semana de vacaciones eso ya sí es una real utopía sino que tenemos que seguir endeudándonos y toda la ciudadanía vasca

infraestructuras de las que solamente podrán beneficiarse las clases más privilegiadas y esto señoras y señores

es lo contrario a lo que yo estudié en su día como redistribución de la riqueza

redistribución de la riqueza era un arma justa y de cohesión social

comienza en la forma en que se generan los recursos públicos es decir en un sistema fiscal justo y equitativo donde los que más ganen paguen más a veces nos surge la duda si los partidos que sustentan el gobierno se olvidan de esto o sencillamente

ahora como la troika está devolviendo al partido popular los favores que le debía

para que no se resientan nuestros gastos corrientes y así mantener la estabilidad presupuestaria así entre el gobierno vasco y

y también es cierto que ustedes se ajustan a la legislación vigente y que la ley os permite aunque no os obligue

generales de dos mil dieciséis sin embargo nosotros vemos que para que nuestro voto fuera favorable faltan muchos datos y explicaciones en el mismo como el mismo señor damborenea ha dicho viene sin anexo

ha sufrido una reducción de cuatrocientos setenta y tres millónes de euros respecto a lo estimado y lo que es más preocupante aprobado por el consejo de finanzas públicas en consecuencia las aportaciones de las diputaciones forales se han estimado en trescientos veinticuatro millónes de euros menos de lo considerado en los ingresos del ejercicio dos mil dieciséis sin embargo

un problema de suelo de ingresos lo que ustedes proponen es aumentar el techo de gasto y acogeros a este nuevo margen ofrecido por el estado a la comunidad autónoma de euskadi uno de los problemas que esto conlleva es que simplemente

de la estabilidad presupuestaria pero no nos decís en ningún momento para qué se pretende usar ese endeudamiento como comprenderán ustedes

y ampliar así el endeudamiento anual previsto en

desde elkarrekin podemos no somos en ningún caso partidarios del aumento de déficit ligado al lema de la estabilidad presupuestaria sin duda alguna

de ampliar en más de trescientos veinticuatro millónes de euros el saldo máximo de endeudamiento anual a menos de diez días nueve exactamente de que acabe dos mil dieciséis es como mínimo pues extraño a primera vista

porque no hay más que mirar los acontecimientos acaecidos en el año dos mil dieciséis para darse cuenta del porqué y es que había elecciones autonómicas

a cada año de elecciones autonómicas le precede la aprobación de una ley presupuestaria altamente electoralista y cómo no expansionista dicho de otra manera

le precede la aprobación de una ley presupuestaria totalmente irreal por ello lo que desde elkarrekin podemos creemos es que habría que hablar seriamente sobre las decisiones que toma el consejo vasco de finanzas públicas y sobre los reiterados errores de las diputaciones a la hora de hacer previsiones de ingresos y para ello desde nuestro punto de vista lo más interesante sería hablar de una verdadera política fiscal

hablemos de un suelo de ingresos y no de un techo de gasto señoras y señores del partido nacionalista vasco y del partido socialista la siguiente

vez de una burda manera de parchear el problema momentáneamente escucharemos a nuestros junteros y a nuestras junteras comentarnos habéis llevado a las distintas diputaciones por ejemplo la eliminación de una batería de deducciones fiscales regresivas o por qué no una batería

ha dicho pese a que los socialistas son conscientes y coherentes en todo parece que son conscientes y coherentes en todo menos con sus ideales no lo sé aunque bueno lo de los impuestos verdes bien pensado lo dejamos un poquito de lado yendo en la cuerda de lo que he comentado antes de la incineradora y de ver que vuestros

pero por qué no si prefieren pueden meter mano en las desgravaciones del impuesto de sociedades pueden meter mano en la progresivización del irpf o en ese fantasma que en euskadi conocemos como impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas

y me gustaría saber si el gobierno tiene alguna opinión consensuada sobre este impuesto sobre cómo se llamará finalmente o si como no me extrañaría nada se va a eliminar alguien de sus gobiernos en las diputaciones se ha parado a analizar el impuesto de sucesiones en gran bretaña

les gusta decir que nos acercamos a sus parámetros pregunten a sus expertos en fiscalidad a ver qué pagan los que reciben por herencia en estos estados

seguro que no es el uno coma cinco fijo como aquí es más en gran bretaña está en el cuarenta por ciento decía louis brandeis

sino juez de la suprema corte de estados unidos entre mil novecientos dieciséis y mil novecientos treinta y nueve que podemos tener democracia o riqueza concentrada pero que no podemos tener ambas a la vez y para ello desde elkarrekin podemos tenemos claro

es una política fiscal que verdaderamente sea progresiva y la cual hoy en día está en sus manos señores del partido socialista y del partido nacionalista vasco y nosotros lucharemos para que no falte democracia en nuestra sociedad

de una mayoría social no esté en manos de una minoría privilegiada

el primero sería eliminar la evasión el fraude y la elusión fiscal que parece lógica pero para ello hay que dar pasos si realmente queremos acabar con ello y este punto también haría reír a más de uno y de una en esta sala si no fuera por poner un ejemplo donde más se incrementó hace dos años la inversión extranjera española

el segundo punto sería que de una vez por todas intentemos convergen con europa con todas sus consecuencias

para nosotros y nosotras pasa sin duda por conseguir un suelo de ingresos adecuado que permita no endeudar a toda la ciudadanía vasca

cosa casi imposible hoy en día cuando la presión fiscal

y la de euskadi se encuentra en el veinte coma dos

siendo la presión fiscal de euskadi poco más del setenta y cinco por ciento europea por poner ejemplos claros se ve como suecia o dinamarca que financian buena parte de su estado del bienestar con impuestos generales pues

que casi todos los nuevos estados miembros de la unión europea como pueden ser polonia hungría en las antípodas supuestamente pues tienen una presión fiscal mayor que nosotros y que nosotras y como dicen la mayoría de los informes el hecho de que la presión fiscal sea sustancialmente más baja que la media europea

altamente improbable que sin aumentos de impuestos se pueda retornar a los niveles de recaudación previos a la crisis

nadie niega que el crédito sea necesario para realizar una política expansiva y que toda la ciudadanía se beneficie de ellas pero debemos usarlo con cabeza

no entendemos un crédito que no sea repercutido directamente en una inversión realmente productiva es decir no entendemos un crédito que no sea invertido en asuntos de interés público de una mayoría social no entendemos por ejemplo que el ochenta por ciento de la inversión del gobierno vasco vaya directamente al tren de alta velocidad además estoy seguro

en la que tratarán el tema del tren de alta velocidad entre otras cosas porque ambos se necesitan por ello

que no dice en qué se pretende invertir estos más de trescientos veinticuatro millónes de euros y que pide simplemente un cheque en blanco

y la ciudadanía vasca necesita más no podemos admitir un proyecto de ley donde no se ponga para qué ni porqué hace falta más transparencia

su mala gestión de los últimos años necesitamos saber también entre otras cosas las inejecuciones presupuestarias que son una causa más de su error presupuestario y sin duda pedimos que no nos enfrasquemos en las aprobaciones de presupuestos irreales

en los ingresos dejemos de jugar con la ciudadanía y sobre todo no endeudemos más a esta comunidad autónoma de los

hoy en día alrededor del diez por ciento va destinado a pagar la deuda contraída y nos preguntamos si es necesario ampliar esta para así hipotecar los futuros presupuestos y nosotros y nosotras creemos que no el uno por ciento más rico del planeta ya tiene tanto como el noventa y nueve por ciento restante

del que tanto les gusta hablar a ustedes euskadi no es una excepción y nosotros les preguntamos si se ha dado esta tendencia en los ingresos por qué las rentas del trabajo los asalariados con nómina

por qué declaran tres veces más que los empresarios que les contratan o que las rentas del capital los sindicatos lo llevan denunciando décadas

y la siguiente y última pregunta que nos planteamos es qué pasará en dos mil diecisiete como bien he comentado antes revisaremos las decisiones del consejo vasco de finanzas

y erróneas previsiones de las diputaciones forales espero que las siguientes previsiones de ingreso que se presenten serán dentro de dos meses más o menos

y que no estén firmados por alicia en el país de las maravillas y que bajemos de una vez a la tierra

el cumplimiento de los mismos no se basen en un cuadro de monet que dejemos el impresionismo a un lado y andemos un poquito hacia el realismo horregatik

sí muchas gracias señora presidenta señora gorospe las previsiones se basan en datos de años anteriores efectivamente

legislaturas que han empezado con un proyecto de ley como este dos

y otra la del señor patxi lópez porque el agujero

del presupuesto y eso venía del gobierno anterior que era del señor ibarretxe

esta es la segunda vez que lo conozco y yo lo que le estoy diciendo es este año ha pasado esto y es que el año pasado pasó lo mismo pero como no había más capacidad de endeudamiento

señor bollain yo no he dicho que esto sea un cheque en blanco a nosotros no damos cheques en blanco a nadie

lo que he dicho es que nosotros lo vamos a apoyar para que se garantice que este año a diferencia del año pasado sí se cumplan las inversiones y se gasten esas inversiones porque nos tememos que si no ocurrirá lo mismo que ocurrió el año pasado y yo no sé si va a coincidir mucho con usted o no pero claro a mí yo cuando usted me dice

debe ser para invertir para invertir para invertir no para pagar gasto corriente y por lo tanto todavía es posible que nos pongamos usted y yo de acuerdo en que hay excesivos gastos corrientes y en algún caso es posible que hasta nos pongamos de acuerdo en cualquier caso le diré

la y se financia al margen se financia contra cupo

contra los presupuestos del gobierno o la emisión de deuda del gobierno y por lo tanto si lo que le preocupaba era lo del ave o tav pues olvídese oponiéndose a esta ley

y en cualquier caso le repito nosotros estamos de acuerdo con ustedes emitir deuda es malo deber dinero es malo luego siempre hay que devolverlo y llevamos una carrera bastante mala en los últimos años en las últimas dos legislaturas

y como hace cinco o seis años

en poco más de ocho años y por lo tanto eso no es bueno porque siempre hay que devolverlo y

le repito y le reitero que lo hacemos para garantizar las inversiones y en cualquier caso que pasen todos ustedes una feliz navidad eskerrik asko damborenea jauna corcuera andrea

vamos a ver señor bollain yo creo que ha venido usted aquí hoy a contarnos un cuento y una película que no era ni el lugar ni el momento y le voy a explicar por qué y creo que además voy a ser breve

el tema de la y vasca como decía el señor damborenea va con cupo

en segundo lugar nos achacaba a nosotros el que no éramos coherentes con nuestros ideales

que apoyar unos presupuestos en los que hemos presentado una serie de propuestas sociales sociales ir adelante con ellos y hoy llega el momento de apoyar la ampliación

porque como ha habido menos ingresos algunas de esas partidas pueden quedarse sin ejecutar y en un cajón

vayamos al endeudamiento para poder llevar a cabo esos presupuestos que nosotros sí aprobamos sí aprobamos en diciembre del año dos mil quince por lo tanto eso de que vamos a ir a una reforma fiscal sí sí oiga pero es que hoy no venía ninguna reforma fiscal no vamos a ir a ningún endeudamiento entonces qué hacemos dejamos

luz y gas en un cajón porque no hay dinero dejamos cuestión de la calefacción en los colegios sin pagar porque no hay dinero es que no va a haber trescientos veinticuatro millónes de euros según el consejo vasco de finanzas

y lo verá usted dentro de unos pocos meses pero podemos hacer mucha teoría leernos todo lo que nos hayan dado quienes se consideran gurús del tema fiscal pero no ser prácticos y en definitiva no ayudar a la gente y sabe usted que los presupuestos sirven en definitiva

para fomentar el empleo para el mantenimiento de las políticas sociales para una mayor cohesión social en esta sociedad tan dividida y tan desigual

hoy acudir al endeudamiento porque hay que sacar trescientos veinticuatro millónes de euros para poder hacer lo que al menos los socialistas aprobamos y apoyamos en un presupuesto y no diga que no porque los ingresos por política fiscal no aparecen porque sí

abrimos un cajón y encontramos el arca con el tesoro que no que los ingresos por política fiscal ya están establecidos en el presupuesto y esos no van a dar más de sí

del consejo vasco de finanzas esos son los que hay que sufragar de alguna manera lección básica de presupuestos así que menos hablar de ideales menos hablar de incoherencias cuando algunos aquí hemos estado batiéndonos el cobre por realmente llevar a las clases más perjudicadas y más vulnerables las soluciones a sus problemas y a sus necesidades

a ver si tiene la oportunidad de hacer lo mismo en esta legislatura y en estos cuatro años de legislatura que están por venir

y muy satisfechos de haber apoyado los presupuestos de esta cámara de este parlamento como le decía un recorrido

y con este presupuesto dos mil dieciséis treinta y cinco millónes de euros que han paliado muchas pero que muchas necesidades

para que esas necesidades se hubiesen visto cubiertas nada más y muchas gracias

seguir avanzando durante algunos años bollain jauna momentu batzuetan ez dut jakin

zer izan den esan duzu no vamos a permitir que sigamos endeudándonos ahora dicen que sí porque

bai bai hori esan duzu ahora dicen que sí porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades

ojalá tuviéramos más para poder gastar más pero no vamos a gastar más de lo que tenemos y vamos a gestionar con rigor y responsabilidad

aipatu izan duzu que quieren una política de redistribución de la riqueza que aquí no se hace mire aquí se hace una política progresiva y equitativa dirigida a la redistribución de las rentas por una doble vía una por la vía de ingreso porque nuestro sistema fiscal es exactamente progresivo y se

tributos e impuestos aquellos que rentas más altas tienen y su objetivo es la equidistribución de rentas una distribución más equitativa y todo nuestro presupuesto va dirigido también a la equidistribución de la renta por vía del gasto treinta y seis por ciento más en políticas sociales un veintitrés por ciento del presupuesto se destina a

usted haga cálculos señora arana no sé si usted está también acompañando en el debate el veintitrés por ciento a políticas de educación y en políticas sanitarias

son las que se destinan más de mil quinientos ochenta euros por persona

rentas no solo por la vía fiscal como ustedes analizan que es el raca raca que han aprendido también por la vía del gasto

que esté de acuerdo conmigo pero lo de cheque en blanco tú has dicho y que no hay anexo y que no se sabe para qué se va a gastar

lo aprueban porque es un acuerdo entre montoro y el gobierno vasco no hay más sobre el endeudamiento yo no he dicho que sea malo endeudarnos

es que en elkarrekin podemos nadie niega que el crédito sea necesario para realizar una política expansiva pero que hay que usarlo con cabeza y que repercuta en políticas y en asuntos de interés público para una mayoría social no para una minoría privilegiada

porque yo no he dicho en ningún momento lo que usted ha dicho que lo de la mochila eso igual es el problema y el problema es de suelo de ingresos no de techo de gasto repito de suelo de ingresos las previsiones del consejo vasco de finanzas públicas que se hicieron adrede sin ajustarse a la realidad a las presiones de la mayoría de los indicadores ahí reside el problema no hay que sacar trescientos veinticuatro millónes de euros

con unas previsiones erróneas y sobre fiscalidad

el informe que se hizo que se le pidió a ignacio zubiri para hacerlo

adibidez el impuesto de sociedades por encima o igual a la media europea

el tipo impositivo de la comunidad autónoma del país vasco el veintiocho por ciento es algo superior

pero se encuentra en la tendencia dominante que es el intervalo en todo caso en el año dos mil ocho y se repite

era donde menos se recaudaba por el impuesto de sociedades aun teniendo un tipo ligeramente superior en promedio se recaudaba un treinta por ciento menos

la baja recaudación pone de manifiesto dos cosas la importancia de los incentivos que se dan y sus deducciones y probablemente del fraude y eso es lo que tenemos que atajar y donde se nos van muchísimos millónes de euros

lege moldaketa desde euskal herria bildu hemos repetido una y otra vez que este gobierno

para responder a la realidad económica y social y a los retos estratégicos de país

para hacer unos presupuestos que atendieran realmente a las necesidades de la sociedad vasca desde euskal herria bildu hemos repetido una y otra vez

no es válida que se queda corta que no cumple con los objetivos que

y lo que aún es peor que ni siquiera cumple con los objetivos de recaudación que ustedes mismos han fijado

el límite de endeudamiento una modificación que viene motivada por la revisión que el consejo de la unión europea realizó a la senda de consolidación fiscal

ha tenido a bien repartir en parte a las comunidades autónomas porque señorías una vez más lo que se nos presenta como fruto del acuerdo bilateral entre la administración vasca y la administración del estado

casi con orgullo como plasmación de la autonomía fiscal y financiera que contempla el concierto económico no es más que la traslación

previamente a las comunidades autónomas de régimen común una vez más el gobierno vasco nos presenta como un acuerdo lo que no es más que una imposición una más y ya van demasiadas gaur

del que hablaremos hoy hay tres cuestiones que debemos tomar en cuenta

es que la tramitación se está haciendo sin garantías sin transparencia y con nocturnidad la segunda es que el proyecto presentado es débil es muy débil

que para nada despeja dudas acerca de la viabilidad y los problemas medioambientales y la tercera tal vez la más importante es que la insistencia

es un error estratégico en lo energético pero también en lo político y de primer orden porque este proyecto

para qué para perpetuar el modelo energético fósil actual en vez de poner la brújula y los recursos públicos mirando a la necesaria y urgente transición energética por eso pedimos hoy que se retire el proyecto armentiamenos dos mientras no haya una justificación técnica convincente

que se desarrolló la legislatura pasada que se cerró en falso sin conclusiones y que seguramente nos dirían que el dinero público hay que destinarlo a proyectos de energía renovable

basada en la transparencia la eficacia la participación y la evaluación de resultados baina gardentasuna esateaz gain praktikan jarri beharreko zerbait denez

entre dos legislaturas para moverse en la oscuridad no habrá declaración de impacto ambiental no habrá fase de alegaciones ni habrá fase de información pública

esto es participación esto se va a dar por bueno

la alternativa cero supone renunciar a la potencial utilización de recursos energéticos propios y también

y además de esto el informe se atreve a mencionar incluso los beneficios del proyecto respecto al cambio climático aunque la sorpresa el argumento más inverosímil saltó ayer en el ayuntamiento de vitoria cuando el socialista

de no sacar el gas si pretendíamos utilizar un candil

un candil no sé si os recuerda a algo pero a mí me recordó

yo ante semejante ciencia evidentemente no tengo argumentos nosotros no baina

alternativa uno dio una posible alternativa recurrida técnicas de estimulación siendo actualmente la fracturación hidráulica fracking la más indicada para este tipo de formaciones

en estados unidos en china y tal debido a la repercusión social que hay en estos momentos sobre el fracking se descarta su utilización en este primer pozo de armentiamenos dos eso dice el fracking

utilizada masivamente con éxito se descarta en estos momentos por la repercusión social por nada más eta hau jarri eta gero

no estamos hablando solamente de un pozo de exploración es una manera entera de entender las cosas lo que hay en juego no queréis entender que la transición

hacia el gas la transición es desde el gas y hacia las energías renovables pero parece que esto os da igual

por lo de siempre con los de siempre y para lo de siempre aunque no va a funcionar

buenos días presidenta consejeros señorías

para fijar la posición de nuestro grupo referente a la iniciativa que presenta eh bildu con relación al proyecto de exploración

en el municipio de vitoria eh bildu ha presentado en poco más de un mes tres iniciativas en torno

en tres instituciones afectadas ayuntamiento de vitoria juntas generales de álava y parlamento vasco tres iniciativas diferentes en los planteamientos contradictorias en algunos casos y difíciles de comprender en el planteamiento y les digo por ejemplo en juntas generales de álava

de bildu con otros grupos pedía el cierre

pedía la retirada del expediente de exploración

llega su iniciativa a esta cámara y se olvidan de instar al gobierno al cierre de shesa y de instar al gobierno

no dicen retirada del proyecto dicen que se suspenda la tramitación hasta que les den una explicación técnica lo que viene a ser

pero bastante cómodo bastante cómodo porque no especifica qué profundidad tiene que tener la explicación técnica cuál es la explicación técnica que usted le satisface

o vale cualquier explicación técnica señor otero le veo una deriva

y además que no se complementa el discurso que usted hace con la iniciativa que presenta aquí

no se corresponde vamos a ser serios y si queremos pedir algo lo escribimos como tal y si no porque ustedes vamos a ver yo puedo hilar esto como cómo acabamos enla anterior legislatura el debate de energía

presentando iniciativas de energía en esta cámara que realmente lo que quería era un debate sobre el modelo energético que tiene gracia pasar cuatro años y no presentar ni una sola iniciativa sobre modelo

para decir que realmente era lo que él quería pero es que a ustedes qué les pasa que lo vimos en el tratamiento de residuos en gipuzkoa cuatro años haciendo oposición a las juntas generales de gipuzkoa con el tratamiento de residuos llegan ustedes al gobierno cuál era su modelo señorías

no tenían modelo y en esto les pasa lo mismo no tienen modelo o no se ponen de acuerdo en cómo presentar el modelo

no conocemos una propuesta seria de eh bildu sobre la transición energética y el modelo energético por lo tanto señor otero sean serios

no es lo que pidió en juntas generales de álava ni lo que decía en el ayuntamiento en el ayuntamiento hablaban de fracking creo que estaban despistados pero hablaban de fracking directamente es así me he leído las comparecencias y las explicaciones por lo tanto le digo cómo empezó

señorías realmente ustedes enredan pero no tienen un planteamiento y mientras tanto los señores del gobierno encantados

porque pasa el tiempo el señor urkullu en su política zen no quiere ruido hasta que señorías se acaba el periodo de control del gobierno y efectivamente como usted ha dicho es cuando se ponen a trabajar

curiosa manera de trabajar de un gobierno que dice que quiere ser transparente curiosa manera y señorías se ponen a trabajar y qué vemos pues vemos que nos traen o piden una autorización para explotar

que ya fue explotado ese entorno hace veinte años nosotros desde el grupo popular entendemos que la exploración de hidrocarburos se debe hacer desde el cumplimiento de la normativa medioambiental respetando el entorno natural los espacios protegidos los acuíferos utilizando las mejores técnicas posibles que están a disposición en cada momento

y de transparencia y digo sostenibilidad económica porque esta exploración nos va a costar veintisiete millónes de euros

todo muy cómodo sin concurrencia abierta para que otras empresas puedan optar a estos trabajos por qué no por qué lo tiene que hacer shesa

por qué veintisiete millónes por qué no diez o berrogeita hamar no sé hay alguna explicación no conocemos

ya utilizada como les he dicho en este entorno hace veinte años que no dio resultados de rentabilidad

y por qué va a dar ahora resultados de rentabilidad tenemos algún dato

esto haya cambiado no así que señorías dudas todas dudas todas por qué

dos mil diecisiete siglo veintiuno no utilizamos las técnicas

las técnicas que utilizan las empresas energéticas

que es una simulación que no hay que perforar técnicas que no hay que perforar para saber cuáles son las condiciones

no se utiliza eso no está shesa en condiciones tal vez de utilizar esas técnicas

que son simulaciones de perforaciones que hacen que cuando uno se pone a explorar se ajuste muy a la realidad

por qué no se utilizan esas técnicas señorías esta actuación del gobierno no es razonable carece de sentido común

en definitiva como les decía transparencia algo que no le gusta a este gobierno y menos en estos asuntos cómo es posible que estemos aumentando la deuda como lo acabamos de aprobar y derrochemos porque creo que con los datos que tenemos es alegremente veintisiete millónes de euros o no es derrochar señorías igual no es derrochar igual lo que vamos a hacer con esto es sacar determinados stock de determinados materiales que están almacenados en determinadas empresas díganoslo

nos lo cuenten yo espero que el señor grajales nos lo cuente porque igual ere ese el objetivo de la actuación digo no sé

en qué está pensando el gobierno cuando mueve este proyecto señorías nosotros presentamos una enmienda a esta iniciativa de bildu

extracción de hidrocarburos de exploración

porque señor otero necesitamos un mix energético que nos garantice que

quiera empezar a trabajar el lunes a las seis de la mañana

y para eso necesitamos y el gas es necesario otra cosa es que seamos responsables

yo estoy con usted que shesa creo que hoy no es operativa no sé si lo fue

no hoy no la necesitamos y yo si ustedes traen una iniciativa de

la apoyo ahora mismo pero ahora mismo porque creo que no es operativa

y este expediente como les digo tiene todas las dudas del mundo y además es que el gobierno ha empezado ya con cierta soberbia

a las preguntas eso me parece soberbia y me parece una manera muy osada de empezar la legislatura muy osada por lo tanto señorías

que se activen las medidas que se aprobaron en la estrategia de cambio climático que es una estrategia muy buena y que se complementó en esta cámara y que yo creo que tiene cosas interesantes además instamos al gobierno vasco a que desarrolle la normativa necesaria para impulsar la transición energética hacia el desarrollo

que por otro lado es lo que está marcando la comisión europea en el paquete legislativo que ha puesto sobre la mesa para debate y también

a que desarrolle una campaña de sensibilización de ahorro y eficiencia energética así como de las bondades del uso y fomento de las energías renovables señorías porque la luz la energía más barata

y aquí no se hace caso el otro día podía leer un informe donde decía que si cada ciudadano hiciéramos un gesto y tuviesemos conciencia de lo que es ahorro energético se podría ahorrar un setenta por ciento de la energía que consumimos oiga no es broma

si me permite un momento para decir que nuestro grupo a la enmienda del grupo nacionalistas vascos pues no va a votar porque nos parece mucho más completa nuestra iniciativa yo les animo a que nos voten la iniciativa que nosotros en la enmienda hemos presentado

de transacción una propuesta de enmienda de transacción pero no he podido aceptarla porque era

y es que realmente nuestra iniciativa nuestra enmienda de transacción es muy completa y creo que recoge cosas muy sensatas que este

y las debería tener sobre la mesa por lo tanto si ustedes van más allá del ego de mi iniciativa creo si son sensatos votarían
nuestra enmienda a la iniciativa nada más muchas gracias eskerrik asko ocariz andrea

sí gracias presidenta y buenos días a todos señor otero

usted nos ha traído hoy una proposición no de ley buscando una excusa para hablar de lo que ustedes quieren hablar siempre aunque los socialistas vascos creíamos que este tema estaba zanjado

que el debate de hoy no era fracking bai o fracking ez y usted no nos ha hablado de nada más que de eso porque su iniciativa no dice eso y ha circunscrito toda su intervención a explicar todo lo que ha ocurrido en este parlamento en torno al fracking

ya hemos vivido debates y debates en torno a esto y yo creo que abrir debates zanjados

creo que envenena un poco el tema y creo que debiéramos dejarlo sobre la mesa en este parlamento es verdad que en multitud de ocasiones hemos debatido sobre el futuro energético y esta que les habla en multitud de ocasiones también ha dicho que era una asignatura pendiente

en el ayuntamiento de vitoria al candil se refiere a que ustedes son el no por el no siempre

se plantean parques eólicos no se plantean la implantación de energías renovables no cuando no hay animales

es que prefieren poner palos y cubos como hablaba la señora lópez de ocariz ustedes hablan de transparencia pero aquello fue impuesto

ni transparencia ni convencer al ciudadano por lo tanto a eso se refiere con el candil

ahora nunca nos explican cómo esa ponencia de la que usted ha hablado en su intervención muere cuando muere la legislatura a mí también me hubiera gustado que hubiera tenido otros derroteros pero pasó lo que pasó y en fin

y ustedes en aquella ponencia eran el no no a esto no a lo otro no queremos

algunas fundamentalmente pero cuando llega la hora de poner sobre la mesa

cómo vamos a conseguir que euskadi avance que nuestros ciudadanos tengan las demandas cubiertas ahí ya cuando no no somos técnicos cuando no no somos gobierno cuando no en fin esto hay que estudiarlo hay que acordarlo pero siempre es no señor otero yo también creo que hay que hablar del futuro de la energía en euskadi

con un noventa y cinco por ciento de dependencia y usted sabe igual que yo que euskadi no está capacitada para dar el cien por ciento a través de las energías renovables tenemos que llegar a un mix y a crear la política energética para dar respuesta a lo que hoy demanda la sociedad y ustedes ante eso no tienen respuesta por lo menos tengan la humildad

que entre todos tenemos que pactar esa política pero no cargue siempre contra el gobierno y contra quienes apoyamos determinadas iniciativas usted sabe cómo se desarrolló el tema del fracking

porque es utilizar también a los colectivos y es volver a incendiar un tema en algo que ya estaba tranquilo los socialistas vascos dijimos no habrá fracking en euskadi

no los socialistas vascos dijimos no habrá un euro público para que el gobierno vasco gaste dinero con el fracking hay un euro público para esto

es que no lo entiendo si usted quiere traer una iniciativa para que volvamos a debatir sobre el futuro de la política energética en euskadi tráigala

volvamos a intentar llegar a un acuerdo hombre pero lo que no puede hacer es marear

trae un disfraz para un debate que usted nos quiere traer aquí porque les conviene o porque lo creen populista pero a la hora de la verdad usted sabe que el que más ha zanjado

me gustaría que en su intervención ya nos ha quedado claro todo lo que no quieren

porque como usted comprenderá yo soy miembro de un partido que apoya al gobierno pero yo también quiero dar a la luz y que se encienda vamos que en fin que a mí tampoco me gusta vivir con candil

entonces creo que hay que ser muy serios con este tema y dejar de crear alarmas

cuando nos interesan sobre todo por el tema de la demanda energética que me parece serio que sigamos hablando de eso pero que nunca digamos qué es lo que pretendemos hacer y por qué digo esto

en europa en el mundo sobra la política de la pancarta sobra

que nos ponemos en primera fila y es lo único que sabemos hacer pero a las cámaras

la política que sea capaz de solucionar problemas de los ciudadanos y ustedes son los jefes de las pancartas

además de las pancartas por tanto creo que es la hora de que ustedes se pongan serios con este tema

pues bueno iniciativas en positivo y sobre todo propositivas porque esta cámara usted sabe que en temas como los medioambientales y la energía siempre han estado

amplio son temas que normalmente siempre han llegado hemos llegado a amplios acuerdos entre partidos políticos antagónicos en otras muchas políticas y por tanto no me parece ni adecuado ni sobre todo responsable incendiar demasiado el ambiente cuando este tema usted sabe que estaba zanjado y si cree que no ha hablado del fracking escúchese luego en el video

y le digo como le decía antes en euskadi no habrá extracciones de gas usted ha empezado hablando de la extracción de gas no convencional es que eso no es armentiamenos dos

estamos hablando de gas convencional y luego puede que a usted

al partido socialista obrero español tampoco le gustaba pero las leyes están para cumplirla

el gobierno está cumpliendo la ley porque la ley no obliga

no obliga a eso que usted quiere no lo impide de acuerdo pero no obliga por tanto usted está pidiendo en su iniciativa en el punto uno que es acorde a la ley que es lo que está haciendo la señora tapia en el gobierno vasco y el punto dos usted sabe que no podemos esperar conclusiones de una ponencia que murió con la legislatura

falta de transparencia porque el gobierno actúa entre dos legislaturas y qué quiere que haga el gobierno qué se paralice todo cómo no hay gobierno elegido llega el día que el señor urkullu convoca las elecciones y el gobierno vasco baja la persiana hasta el día que el señor urkullu vuelve a ser elegido en gernika

en el periodo intersesiones se hacen muchísimas otras cosas que forman parte del día a día de la gestión de un gobierno y usted

yo entiendo que puede que no le guste pero me tendrá que reconocer que la ley se está cumpliendo y lo que el señor urtaran dijo ayer en la comparecencia en el ayuntamiento de vitoria fue que él como alcalde de vitoria quiere garantizar que lo que se vaya a hacer siempre lleve las condiciones ambientales adecuadas

lo que sobre todo tiene que ver con el municipio de vitoria por eso le pregunta el ministerio a él y desde luego creo que es lo que se ha hecho siempre

creo que ningún partido político ha hablado de que se incumplan ni las medidas técnicas ni las medioambientales ni las económicas y desde luego no considero que el señor urtaran pues bueno un chalado que pretenda

que él legítimamente gobierna por lo tanto para concluir decir que usted nos ha querido traer un tema que en el que se siente cómodo pero que está zanjado euskadi es un territorio libre de fracking libre de fracking

y usted sabe todos los años que nos llevó al acuerdo que al final llegamos o no

que quiere que hablemos del futuro energético del país traiga la iniciativa y hablemos de eso eso sí pero con propuestas

porque puede haber una de esto no y al lado esto sí digo para ver un poco que es lo que piensa eh bildu del futuro de este país porque es verdad que aquí con candiles no quiere vivir nadie pero hay algunos que nos dedicamos hacer política para plantear propuestas que es a lo que nos dedicamos y en ese acuerdo que usted hablado que ha firmado el partido socialista de euskadi con el partido nacionalista vasco

lo firma un partido que fue el partido que primer gobierno que hizo el gobierno en abierto no lo hizo eh bildu en gipuzkoa lo trajo el partido socialista de euskadi a ajuria enea

pero es que además de transparencia se habla de pobreza energética se habla de que el fracking ya no es una realidad en euskadi se habla del futuro energético

por lo tanto fracking no para todos fundamentalmente porque estamos obligados por ley hasta que un tribunal

blindado tenemos el territorio pero es que yo confió en el estado de derecho señor otero igual usted no

hay una ley y luego están los trámites para que haya gobiernos que pretendan bueno levantar las leyes

pero de momento la ley está vigente y usted sabe que euskadi es un territorio libre de fracking

que no le gusta lo acepto que el gobierno vasco está cumpliendo la ley sí por lo tanto a partir de ahora críticas políticas yo entiendo que todas

eso sí trayendo también alguna propuesta para empujar en el futuro del país

egitura horren barne dago lehen con los de siempre esaten zenuen egia da con los de siempre

por tanto como decía la primera obligación y responsabilidad de un gobierno y de un país en materia energética es conocer los recursos de los que dispone y en segundo lugar garantizar

en nuestra opinión es deber de las administraciones públicas

y no renunciar en ningún caso al conocimiento pero hemos dicho alto y claro que ese análisis ha de ser respetuoso con el entorno

y el medio ambiente la estrategia vasca de energía ha establecido claramente sus objetivos caminar hacia el consumo cero

y haciendo del gas una energía de transición beraz otero jauna ikusi horretan ere ados gaudela una transición que hay que afrontar con la responsabilidad de garantizar el consumo garantizando el suministro energético

sobre nuestros propios recursos y la posibilidad de explotarlos y todo esto en un territorio en el que se consumen tres mil millónes de metros cúbicos de gas al año y se produce cero

en un territorio absolutamente dependiente en materia energética estamos por lo tanto lejos muy lejos

los objetivos más ambiciosos no sé si algunos llegaremos a verlos me temo que no

cien por ciento renovable con un periodo de transición de ochenta y cinco años en el que se va a tener que potenciar el uso del gas natural respecto al carbón y al petróleo los más contaminantes y los que efectivamente hay que eliminar del mix energético que este país necesita por lo tanto dentro de los hidrocarburos el gas natural es el principal objetivo técnico de la exploración que realiza la sociedad de hidrocarburos de euskadi al que considera o al que se considera como fuente de energía más limpia

que hay que recordar una vez más como decía anteriormente que cuentan con limitaciones propias

como tal energía de transición por lo tanto encaja plenamente en la estrategia energética de euskadi dos mil treinta pero no solo en euskadi a nivel global se va a potenciar el uso del gas natural porque es el hidrocarburo de combustión más limpio y eficiente y por lo tanto el más sostenible desde el punto de vista ambiental

como decía libera aproximadamente la mitad de ce o dos que el carbón y un treinta por ciento menos que el petróleo la disminución de emisiones que conlleva la sustitución

en consecuencia a mayor sustitución mayor impacto ambiental positivo obviamente sigue impactando pero es que todavía no hemos descubierto algo que tenga una incidencia cero verdad por otro lado

de un recurso autóctono de un recurso local de gas natural tendría indudables ventajas ambientales ya que se evitarían por una parte los costes como decía antes refiriéndome al precio y a los otros es decir se evitarían los costes ambientales

especialmente en el caso del gas licuado evitando la importante emisión equivalente de ce o dos derivada de los procesos de licuefacción

se hablaba en intervenciones anteriores del candil claro que no vamos a andar con un candil seguiremos trayendo lo de fuera en la medida que no podamos utilizar el autóctono seguiremos trayendo lo de fuera y yo creo que en muchos casos eso es en alguna manera no sé si llamarle doble moral ecológica pero desde luego

sí que hay detrás de este planteamiento es decir aquí no ojo no tocar ya lo traeremos de

y parece como no que lo sufran allí como si no compartiesemos la misma

además necesitamos el gas natural además de porque lo consumimos

necesitan una fuente alternativa que asegure el suministro en los periodos de no generación es decir nocturno para la solar de calma de viento para la eólica

las renovables necesitan para su utilización en el presente y para su futuro desarrollo y funcionamiento que sin duda acabará produciéndose una fuente energética limpia como el gas natural

es demostrar si es posible obtener resultados con rentabilidad positiva mediante las mejoras técnicas de perforación disponibles en la actualidad

baina orain baimena eskatu da putzu bakar baterako esto es un sondeo si usted tiene razón seguramente

del anterior o mejor dicho de los catorce anteriores porque en este mismo ámbito ya ha habido

catorce sondeos desde el año cincuenta y cinco hasta el año noventa y siete en una época en la que

y el acuífero de subijana de momento sigue ahí el proceso administrativo sigue su curso

cuál es la resolución del ministerio y a partir de ahí veremos cómo sigue este procedimiento yo insisto en que hay que conocer los recursos

investigar hay que investigar para conocer y conocer para decidir

ya desde principios del siglo veinte se han realizado múltiples perforaciones

y saben qué que casi nunca se ha encontrado nada que merezca la pena son yacimientos menores difíciles de explotar y aún más difíciles de rentabilizar

nada de nada durante todo este tiempo quizás el yacimiento más prometedor ha sido el de campo castillo que es donde se pretende acometer el sondeo armentiamenos dos que hoy se trae a debate

este yacimiento es nuevo como ha dicho el señor grajales han sido ya más de catorce sondeos al igual que no lo son los accidentes y los errores cometidos al tratar de explorar su potencial de producción gas por ejemplo no sé si sabrán que en mil novecientos sesenta el sondeo castillomenos uno provocó un escape de gas a una vaguada cercana

tuvo que comprar cocinas eléctricas para el vecindario ante el riesgo de explosión debido a su escape solo un año después en mil novecientos sesenta y uno

se produjo un grave error de operación durante la perforación

el acuífero de subijana con la formación de calizas de gárate por suerte

que la formación de calizas de gárate y el agua inundó la formación si hubiera sido al revés el gas hubiera entrado en el acuífero saben ustedes

suministro de aguas subterránea más importante de toda araba

sabían ustedes que el pnv exigió en dos mil doce

en caso de sequía y cito textualmente treinta años después ya en mil novecientos noventa y siete y sigo hablando del mismo yacimiento

no se pudo completar se derrumbó parte de la formación rocosa balmaseda durante la fase de la perforación afectando al pozo principal y aún así y a pesar que no es lo habitual ni lo deseable

bajo la figura de prueba evitando así pagar los cánones estipulados por pasar el permiso del estatus de investigación a producción

la sociedad pública de hidrocarburos de nuestro gobierno quienes tomaron esas decisiones veinte años después

es como si el tiempo no hubiera pasado para este gobierno como si no hubiéramos aprendido de los errores ya cometidos cincuenta años después seguimos enterrando dinero público en proyectos del pasado que no van a solucionar el suministro energético del país pero que sí ponen en grave salud o pueden poner en grave riesgo la salud de las personas

cuya supervivencia depende de que vitoria araba y euskadi mantengan un medioambiente saludable porque a diferencia de lo que se ha transmitido a los medios de comunicación

las reservas de gas ya se conocen perfectamente señor grajales se conoce a la perfección desde hace cincuenta años han sido múltiples los intentos de producir gas y otros tantos los fracasos

y este gobierno han renunciado al uso del fracking como método de prospección de hidrocarburos en nuestro territorio

y estos intereses buscan mantener viva la llama del pasado

y se resisten a pasar una página de la historia que nos ha llevado a cambiar el clima del planeta como nunca antes había sucedido y son estos intereses siempre opacos y casi siempre ocultos los que mueven sus hilos en la sombra

sustituyéndola por una evaluación simplificada que lo que implica es que se evite la exposición pública del proyecto y la presentación de alegaciones ciudadanas y ante esta situación el propio ayuntamiento de vitoria gasteiz consideró que esa decisión supone una merma de la participación social

que puede afectar tanto a sus vidas como a sus propiedades vamos a negarles ese derecho

venden unos datos de producción de gas que posiblemente nunca se vayan a cumplir venden unas expectativas de independencia energética para el país que no son reales

porque si la explotación convencional de gas en araba nunca ha dado resultados qué va a cambiar ahora para que sea diferente

si ninguna empresa privada ha decidido explotar este pozo por qué será sabían ustedes que en mil novecientos sesenta y cuatro en el pozo castillomenos tres en la misma formación

incluso con explosivos y adivinan qué pasó

por qué ahora va a funcionar qué técnicas se van a utilizar y si hubiera algún imprevisto yo pregunto aquí ahora quién asumirá la responsabilidad

ante una amenaza de este calado para la población de vitoria gasteiz sea solo la de invocar en sus enmiendas el cumplimiento de la ley vasca contra el fracking ha dicho la señora rojo que este no es un debate sobre el fracking por qué entonces las dos enmiendas en la totalidad mencionan que se cumpla la ley del fracking

de que por un lado confían ciegamente en que los responsables de shesa velarán para que todo vaya bien pero acaso no ha quedado claro ya que shesa hoy en día es parte del problema y no de la solución acaso nadie se ha preguntado quién o quiénes le pusieron en su día el casco del fracking en la cabeza al señor lópez

no cierre definitivamente las puertas a la energía fósil mientras no dediquemos nuestros esfuerzos políticos y económicos a desarrollar nuestras propias fuentes de energía renovable no habrá esperanza para un cambio real ni en nuestra economía ni en el clima del planeta y así mientras en euskadi vamos a enterrar veintisiete millónes de euros en este pozo armentiamenos dos en alemania hace ya quince años decidieron invertir

de euros en un plan de desarrollo en las energías renovables que les ha colocado a la cabeza de europa

y no necesitaron ochenta y cinco años señor grajales en quince años han conseguido que el veinticinco por ciento de su energía eléctrica proceda del sol y tienen mucho menos que en euskadi y además les ha permitido crear casi trescientos mil puestos de trabajo de calidad y estables

ese plan alemán dicho sea de paso se aprobó gracias a la presencia de los verdes en el gobierno de alemania como no porque también hay alternativas y en elkarrekin podemos tenemos esas alternativas hoy en pleno siglo veintiuno no merece la pena seguir gastando dinero en saber si hay algo de gas

metros bajo nuestro suelo cuando ya sabemos que aquí en la superficie disponemos de energía limpia y barata que solo necesita del suficiente impulso y de la ambición política

y no prestarle a las energía renovables es darle la espalda al futuro

porque a nuestro juicio es la más coherente tanto para el futuro del clima como para proteger hoy en día a la ciudadanía de gazteiz de este nuevo despropósito fósil

contestar todo evidentemente es una pena porque hay tema

quien cuando le preguntaban acerca de cómo iba a ser la tercera guerra mundial contestaba

yo no se cómo va a ser la tercera guerra mundial lo que sí se es que la cuarta va a ser a pedradas yo lo que quiero decir con esto es que

a lo mejor lo que nos lleva a utilizar candiles es precisamente seguir insistiendo por las apuestas que se están insistiendo acerca de lo que me ha dicho

mencionando el twitter pero yo no se si usted se considera parte de populares de álava

hablaban de que ni se puede invertir veintisiete millónes de euros ni se pueden abrir pozos de cinco mil quinientos metros

de votar una proposición no de ley que va a paralizar el proyecto y después veremos porque si ustedes se abstienen esto va a seguir adelante eso es muy claro en el ayuntamiento de vitoria el señor iturritza dijo que no es de recibo justificar la transición al gas y hacerlo

el uso de sustancias peligrosas la perforación de acuíferos y los productos químicos no se pueden permitir en los montes de vitoria yo no sé que pasa con el partido popular según vamos subiendo de instancia parece que empezamos a tener más problemas para comprender los problemas de la gente no voy a decir mucho más

que mida un poco cuando dice las cosas porque ha dicho una afirmación completamente poco rigurosa vamos a decirlo así que si apagamos

tenemos un ahorro del setenta por ciento yo le recuerdo que el ochenta por ciento de la energía en esta comunidad autónoma se consume

y el transporte así que estaríamos hablando sobre un veinte por ciento de capacidad de acción en todo caso sobre la señora rojo yo he dicho que el debate del fracking está pasado el fracking ya pasó quien habla de fracking es hidrocarburos de euskadi

quien habla de fracking yo hablo de gas no convencional y el gas es un gas no convencional porque el yacimiento es un yacimiento no convencional

es gas no convencional lo que puede ser convencional o no

tenía la oportunidad de haber sido entiendo que un poco más humilde haberse puesto un poco de perfil yo sé que no es un proyecto suyo

pero es que el psoe está dando bandazo tras bandazo con el tema de los hidrocarburos y las energías renovables y los bandazos los da según si está en el gobierno o está en la oposición

se fueron a texas a sacarse la foto después se pusieron muy en contra y abanderaron la lucha contra el fracking ahora vuelven a estar en el gobierno y ahora vuelven apoyar la extracción del gas no convencional

en la deriva habéis pasado en poco tiempo en poco tiempo de colocar y de haber hecho algo muy bien de colocar al reino de españa

como puntero en instalación de energía renovable y pionero

a ser en la actualidad a tener el papel

de sujetar la maquinaria perforadora del pnv para hacer agujeros y eso tanto en la vida como en la política tiene un nombre

así que lo voy a explicar de otro modo digamos que en esta película lo que venís a ser es

de un proyecto que es a estas alturas completamente quijotesco porque el proyecto es quijotesco aquí lo que está pasando

no se quiere bajar de la burra bnk petroleum se ha ido

ya no existe posibilidad de sacar esto con rentabilidad

lo que pasa que shesa tiene que seguir autojustificando su existencia

es seguir mamando de la teta pública porque no tiene otra posibilidad

nunca explotó un yacimiento en la comunidad autónoma y sigue sin hacerlo entonces lo que no se entiende es que desde este gobierno que el año pasado destinó cero coma dos millónes en generación eléctrica renovable

ahora resulta que vaya a destinar un montón de millónes de euros para ir detrás de este proyecto estamos de acuerdo y termino con esto en el diagnóstico lo que no estamos de acuerdo

está muy bien pero no acordarse de que han estado ustedes cuarenta años manejando la barca

pues es como poco una omisión demasiado grande eta

señor otero nuevamente

no le gustan las políticas de ahorro y eficiencia energética no le gustaron en la anterior legislatura nunca propusieron nada en este tema y aquí tampoco detrás de un proyecto industrial y quien diseña hay personas

hay personas señor otero que no les gusta este tema nunca han propuesto en esta cámara y búsquelo una sola iniciativa de ahorro y eficiencia energética

y donde estamos inmersos el conjunto de los países europeos y del mundo que es la evolución de la política energética lo que llamamos la transición energética eso que tenemos que hacer porque nos comprometimos en la cumbre de parís usted parece que la reconoce en su conjunto

pero dudamos de que ustedes tengan ganas de participar señora rojo para empezar y para que

que el partido socialista de euskadi no apoya al gobierno forma parte del gobierno dice que el gobierno cumple la ley

para qué utiliza la ley que es para gastar veintisiete millónes de euros en no sabemos qué hombre que ustedes desde su concepto

les dé igual en qué se van a invertir veintisiete millónes de euros del erario público pues ya me sorprende que no se cuestione cuál es el objetivo porque el objetivo es la nada

lo ha contado el señor becerra lo ha contado perfectamente es que es la nada es que es enterrar en ciento setenta días a ciento setenta mil euros cada día

tubos y otros materiales oiga ya va a dar de sí

señor grajales señores del gobierno su actitud y el modo de tramitar tiene todos los ingredientes para levantar todas las sospechas posibles y es que ustedes no aclaran absolutamente nada son opacos

no se puede hacer contra el gobierno no hay un solo informe que justifique garantías

un solo dato retrasan las respuestas yo me pregunto como le decía antes qué es lo que ha precipitado

o la tramitación de este expediente que el gas sea una fuente de energía más limpia que otras no justifica que se

en un pozo que no tiene visos de ser rentable nadie duda de que sea una de las energías más limpias

es justificación para que cometan la tropelía de gastarse veintisiete millónes de euros para nada bueno para algunos sí

eso está claro mire desde el grupo popular tenemos

desde el grupo popular apostamos por un modelo energético

alineados con el paquete legislativo como decía antes que la comisión europea ha puesto a debate y a aprobación primer objetivo la eficiencia energética

energía más barata la más limpia es la que no se consume hacer más necesitando menos energía ese es un objetivo y en eso

destinarse parte de esos veintisiete millónes de euros claro que se pueden destinar pero no ustedes

directamente como le decía se pueden hacer acciones de ahorro y eficiencia energética en distintos sectores como la edificación el transporte por carretera el ferrocarril el alumbrado público oiga hay muchas cosas por hacer que aquí no avanzamos segundo objetivo

en el año dos mil treinta españa va muy avanzada esta comunidad autónoma va retrasada ustedes no han hecho absolutamente nada

oportunidades que es que ustedes no las aprovechan menos mal que tenemos una empresa pública oiga que no las aprovechan menos que tenemos el eve oiga que no que es que nos lo aprovecha que no llegamos a porcentajes

normales y gastamos sí gastamos como si no hubiera fin y tercer objetivo potenciar al consumidor en general y especialmente el consumidor vulnerable precios competitivos y precios asequibles y que las medidas de eficiencia

no repercutan en el precio del recibo del consumidor esos son tres objetivos importantes ustedes cuál es su modelo gastar del erario público

y el partido socialista le apoya claro el gobierno

por ambos y ambos comparten ese objetivo señora rojo eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

gracias otra vez presidenta por aclarar señora lópez de ocariz el grupo parlamentario socialista apoya

el partido socialista de euskadi forma parte del gobierno es una cuestión de dialéctica no busque trampas que no que el partido socialista forma parte del gobierno yo formo parte la dirección del partido socialista de euskadi encantada porque creo que es lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los vascos eso como matiz segundo usted dice veintisiete millónes de euros para nada

haga preguntas al gobierno esté vigilante como labor de la oposición porque ustedes sí son la oposición y ya veremos las respuestas que recibe por parte del gobierno pero afirmaciones categóricas

pero vamos hasta ahí que era la intervención que usted ha hecho en este segundo turno pero

que yo creo que se podía haber hecho más que quede claro pero si hay un partido que ha ahogado la política de las energías renovables es el partido popular

revise la política del señor rajoy y hable con los empresarios arruinados

en cuanto a las energías renovables por lo tanto en fin un poquito de decoro cuando se hablan de determinadas cosas

esta cámara bien sabe que soy una defensora del señor zapatero y entonces no le puedo decir más que está acertado en la apreciación que ha hecho si españa no hubiera votado al señor rajoy pues hubiéramos ido por esa línea se hubiera continuado y hubiéramos estado hablando de otras cosas bueno ya sabe el pueblo soberano vota y así estamos y respecto a lo que venimos a hablar hoy bandazos ninguno y es injusto que usted lo diga porque usted sabe cómo se llego al final del posicionamiento político

y usted sabe el señor becerra no esperaba más de podemos que el casco del señor lópez porque siempre que ha hablado con él nunca habla de nada más que del casco y evidentemente está la foto en fin el fracking se hablaba en euskadi usted nos ha hablado del sesenta y uno ya

yo le digo bandazos no usted sabe que cuando el señor lópez con aquel casco del señor becerra hablaba del fracking

técnica medioambiental y económica tres menciones fundamentales que también decía el señor

consejero que ahora no me acuerdo como se llamaba el de industria

y usted y yo hemos discutido siempre de esas premisas jamás el señor lópez dijo sí al fracking y le invito hoy igual que le invité hace ocho años a que buscara en las hemerotecas cuando dijo el pse sí al fracking

es que estamos en otra cosa y usted sabe cómo se llegó a esto una vez de que se trabaja en el tema del fracking

el partido socialista de euskadi empieza a trabajar de la mano de usted para acabar en la ley que hoy tiene euskadi que usted sabe que sin el partido socialista nunca hubiera sido posible

el partido socialista también dejó pelos en la gatera pero hoy hay una ley en la que se miran el resto de comunidades autónomas

ninguno ustedes tendrían que estar encantados de la labor política que llevó el pse en el tema del fracking y usted lo sabe perfectamente

jamás dijo el pse si al fracking hemos sido uno de los protagonistas del texto

y por lo tanto yo le invito a que presente en esta cámara en hemeroteca cuándo algún socialista vasco lo dijo porque no es cierto por tanto creo que debiéramos de hablar cuando menos no faltando a la verdad porque eso es falso y usted lo sabe

con esto de lo candiles que se que a usted le gusta mucho en el debate de ayer del ayuntamiento el pse no acusa a bildu de que queramos utilizar candiles

es que de su política energética nos lleva a los candiles que es distinto porque si vamos cerrando puertas si a todo le décimos que no pero a nada planteamos alternativas

pero pongan sobre la mesa y si usted quiere acabar con shesa traiga una iniciativa

pero no se puede venir aquí a hablar de algo que no viene en su iniciativa original y señor becerra por terminar aquí se ha hablado de fracking

en la parte expositiva y en la justificación de la urgencia quien habla de fracking es bildu

y aquí sorpresas en esta cámara pocas estaría bien que de vez en cuando alguien sorprendiera pero como ya nos conocemos

siguiendo con las grandes citas voy a tirar del gran filosofo

que este puede ser el comienzo de una larga amistad

pero permítame que le diga que no se puede decir una cosa y la contraria en el mismo discurso

no se puede decir bueno no se puede decir una cosa y la contraria en el mismo discurso si no es usted del partido popular que van a discurso por institución

dicen otra aquí y no les quiero contar lo que dicen en el gobierno de españa y porque no me he puesto a ver qué plantean respecto a esto en el parlamento europeo

en cualquier caso creo que en el mismo discurso no se puede decir que aquí no ha habido participación ciudadana y a la vez nos enseñen el famoso informe de los técnicos del ayuntamiento de vitoria gasteiz claro que ha habido participación

no ha habido una participación en la que se permite a todo el mundo que quiera participar participar pero me parece que una participación

instituciones administraciones grupos ecologistas personas afectadas

y creo que es lo que han hecho tanto el ayuntamiento de vitoria como la diputación foral de álava manifestar sus dudas al respecto y ahora tendremos que ver qué sale por ahí en fin le decía que tenemos cuatro años para seguir hablando de esto y que en el camino nos encontraremos y yo creo y espero que además sea para bien si usted además aunque tarde sigue reconociendo la grandeza de xabier arzalluz será mucho más fácil

y al cierre que aunque no se ha planteado hoy directa y abiertamente

de alguna manera ha fluctuado a lo largo del debate yo debo de ser muy raro y debe de ser ese neoliberalismo que nos sale por los poros el que

me hace sentirme raro porque pienso que tener una sociedad pública para investigar en este caso hidrocarburos es un lujo

y con técnicos de primer nivel de hecho es la única empresa de este tipo en todo el estado

que es absoluta garantía de transparencia de máximo rigor y de respeto medioambiental es que si no tuviesemos una empresa pública que se dedicase a esto esto lo harían las empresas que se dedican al tema directamente con el ministerio del partido popular que precisamente no defiende como decía antes lo que hoy ha defendido aquí

en el ayuntamiento de vitoria que si no mirabas podía ser perfectamente alguien a la izquierda y mucho más radical que el señor otero cuando participaba en la plataforma contra el fracking

sea contrario a los acuerdos firmados en materia de cambio climático

dos mil veinte que a su vez está totalmente coordinada con la estrategia vasca del cambio climático y si esto es quijotesco sancho panza soy yo

de podemos me llama mucho la atención además poderosamente cómo ponen siempre de ejemplo alemania de esto alemania de la señora angela merkel es que alemania lleva en los últimos años un montón invertido y han llegado a energía renovables al diez por ciento

al diez por ciento mientras siguen empleando un veinticinco por ciento en carbón

en derivados del petróleo tienen un veintitrés por ciento de gas natural y un diez por ciento en energías renovables que han avanzado mucho claro y siguen en la prehistoria

de derivados del petróleo mientras que aquí

es infinitamente más bajo yo insisto en lo que planteaba en mi primera intervención hay que investigar para conocer

tenemos herramientas para ello y sería una absoluta irresponsabilidad renunciar a ese conocimiento estamos por lo tanto ante un debate en el que debería prevalecer ante todo el rigor científico y técnico y buscar ante todo el bienestar ciudadano eta

hemos oído que dejando aparte el discurso del grupo proponente hemos oído discursos relativamente diferentes

por parte del resto de los grupos coinciden en tres cuestiones importantes

sin embargo creo que no son discursos coherentes y no lo son porque en primer lugar se oponen al fracking

porque a pesar de que esté en la exposición de motivos de la proposición no de ley del grupo proponente

si es una explotación de gas convencional vuelvo a decir es poner la venda antes de la herida hablar de fracking

y yo le digo a la señora rojo que si efectivamente ustedes mantienen esa política

en base al fracking y pregúntese por qué no han sido respondidas las preguntas que se han hecho desde este parlamento al departamento correspondiente por qué no se han respondido en tiempo y forma y se ha pedido una ampliación de plazos si el proyecto ya está definido

en cualquier caso es incongruente que hablemos de defender

promover la lucha contra el cambio climático quemando gas

son totalmente incongruentes y sin embargo el cambio climático sí se combate promoviendo por un lado el ahorro y la eficiencia energética y me encanta escuchar que el partido popular esté

pero también promoviendo las energías renovables y cómo se promueven las energías renovables para que sean realmente efectivas

que aún lo que usted ha dicho no es un diez por ciento es un veinticinco por ciento de energía

para promover las renovables nos hacen falta cuatro cosas voluntad política

decisión política y sobretodo inversión económica evidentemente no podemos desarrollar las renovables autóctonas vascas que también las hay si no ponemos dinero

porque seamos conscientes de que el modelo de transición energética se basa en el ahorro y la eficiencia y se basa en las renovables

de que se necesita el gas como una energía de transición pero cuanto más se invierta en renovables menor será esa transición

y sobre todo no necesitamos el gas de araba sea convencional o no convencional porque este gobierno metió mucho dinero en su momento en una regasificadora

del extranjero que ahora mismo está funcionando hace unos meses a un diez por ciento de su capacidad y se invirtió muchísimo dinero en plantas de producción de energía eléctrica de ciclo combinado y de las cuatro que tenemos en euskadi como mucho está funcionando una y a medio gas por lo tanto ahora mismo el gas convencional que existe en el mercado es mucho más rentable que el gas

y esto no es una cuestión de que sea autóctono o no autóctono lo autóctono que tenemos en euskadi son en muchas o pocas las energías renovables a las que este gobierno ha dado la espalda desde hace mucho tiempo entonces yo les diría por concluir que no pongan la confianza en shesa porque

por parafrasear al señor grajales son treinta años de fracaso tras fracaso y este es un fracaso más que nos va a costar veintisiete millónes de euros a todos los vascos y vascas

a méxico memorias de personas que inevitablemente se entrecruzan con las que quienes hoy huyen de la guerra

de la trata para la explotación sexual de la homofobia y del feminicidio entre tantas otras persecuciones posibles buscando un lugar donde vivir con dignidad memoria de personas que de un tiempo a otro y de un lado a otro muestran al mundo la gran capacidad que tienen para resistir y reconstruirse

hay más de sesenta y cinco millónes de personas que han tenido que huir en busca de refugio es nuestro deber cumplir con la ley

tendiéndoles la mano que nos tendieron a nosotras en el pasado la solidaridad es una característica pero también un deber de los pueblos creemos que solo desde ahí

sea una máxima inviolable irrenunciable hoy de nuevo en este marco de los derechos humanos hemos sido capaces de llegar a un acuerdo por la mayoría de la cámara un acuerdo que muestra dos cuestiones que la mayoría no somos todas y por lo tanto en un marco de mínimos como el que presentamos hoy aquí nos retratamos

o no estamos en esta cámara y por descontado retratamos también las prioridades de las organizaciones de las que formamos parte también

euskadi ha de ser uno de ellos nosotras hemos venido aquí entre otras cosas a contribuir a que eso sea posible persona refugiada

tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza religión nacionalidad

se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país o que

no puede o a causa de dichos temores no quiere regresar a él en esta definición

falta el reconocimiento de la persecución por motivo de género u orientación sexual

no obstante sigue habiendo tareas a la hora de entender este concepto que a nuestro entender son del ámbito de la política y en este sentido

y lo hacemos por varias razones creemos que es fundamental reactivar el intergrupo

porque hay cuestiones que al menos a nosotras nos da mucho para pensar el incremento de los conflictos armados internos las políticas migratorias cada vez más restrictivas de los estados

las nuevas forma de persecución como por ejemplo las que establecen las grandes corporaciones empresariales por la monopolización de los recursos naturales la definición androcéntrica y heteronormativa de los tratados internacionales

hoy esté en peligro pero que además precise de una revisión urgente revisión porque en europa tiene más peso y seguridad jurídica para su cumplimiento

que las convenciones declarativas que regulan nuestros derechos los de todas las personas revisión

y que debe ir avalada por el marco de los derechos humanos siempre y sin cuestionamiento alguno revisión que debe afinar en la definición de persona migrada y persona refugiada

no podemos crear ciudadanía de primera y de segunda y en todo caso no podemos perder de vista que las migrantes no pueden ser menos sujeto de derecho ni tienen menos derecho a vivir con dignidad y que a ellas a todas nosotras los derechos humanos nos reconocen en su artículo trece el derecho a circular libremente a elegir nuestra residencia en el territorio de un estado

incluso del propio revisión del derecho de asilo porque no podemos asistir impasibles a la necropolítica

sin que nadie asuma ninguna consecuencia y lo peor sin que a nadie parezca impórtale revisión

y porque desde luego todas somos responsable y tenemos el deber de aportar desde nuestro ámbito

y en la que todos los seres humanos tengamos derecho a vivir vidas que merecen la pena de ser vividas revisión porque el estado español

y de estas solo aceptó el treinta y uno por ciento lo que supone la concesión doscientos veinte estatutos de persona refugiada porque en el año dos mil quince el estado español ocupa el puesto número trece en países receptores de solicitantes de protección internacional siendo una de las fronteras sur de europa y eso es extraño pero sobre todo preocupante porque aunque es cierto que en euskadi a día de hoy no hay competencias directas en la gestión de políticas migratorias y de asilo hay competencias de las que dependen directamente que las personas tengan derechos o no las tengan por un lado

instando al gobierno estatal a que cumpla sus compromisos instando a europa que proteja las personas

para trabajar desde el respeto a los derechos humanos apostar por la externalización y militarización de las fronteras por cerrarles el paso o condenar a que sean países como marruecos o turquía quienes valoren la protección internacional

no dejará de venir sino que morirá más y pasará peores condiciones por el camino no tienen alternativa para quedarse y no es justo

cerremos las vallas y pongamos muros a quienes han sufrido las peores consecuencias de ese expolio por otro lado es fundamental presionar para que se cumplan los compromisos adquiridos es una vergüenza que habiendo posibilidad y oportunidad acoger a fecha de hoy

de las cuales a euskadi solo han llegado veintisiete es indispensable que nos volquemos en encontrar soluciones para garantizar este compromiso y para garantizar la acogida

y busquemos alternativas como las que ya se están encontrando en otros territorios para que independientemente de quién se lleve el protagonismo o quién se saca la foto demos soluciones a la gente por último

no es normal y espero que así se entienda que desde el año dos mil nueve no haya un reglamento que desarrolle

en este sentido apoyamos y pondremos nuestra capacidad de trabajo en el intergrupo parlamentario por la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y entendemos que la proposición original se ve reforzada por las aportaciones de los otros grupos eskerrik asko por llegar a un acuerdo

por el respeto a los derechos de las personas refugiadas y por el papel que en esto cumple la administración pública vasca garantizando el acceso de todas

a todos los derechos como ciudadanía que son porque aquí residen tenemos el deber de garantizar su acceso al sistema vasco de servicios sociales especialmente cuando por una u otra razón

y por lo tanto su derecho a la vivienda está lejos de ser garantizado

ajustado a su situación y a su realidad garantizando

prestando atención a algunos ámbitos que tal vez precisan tener atendidos y a día de hoy no lo tienen como puede ser la salud mental tenemos también y de una manera transversal e integral el deber de apostar por la educación por una educación pública y de calidad

empieza en la base desde donde realmente podemos hacer algo para que la interculturalidad sea real

en nuestras ciudades algo que gestionemos como la riqueza que supone

tenemos la responsabilidad de crear un marco para canalizar la solidaridad de la ciudadanía que una vez más nos ha dado una lección volcándose en la denuncia de los acuerdos criminales de la europa fortaleza

sabido cómo hacerlo tenemos la obligación de acabar con el discurso del miedo discurso que nos paraliza y nos empobrece con el discurso de ellas enfrentadas a nosotras

entendemos que esto no vende y que puede costarnos votos pero apostamos por una euskadi de todas

una euskadi con memoria una euskadi acogedora para todas las personas acoger se define

pero también puede definirse como valerse de algún pretexto para disfrazar o disimular algo

buenos días muchas gracias presidenta

señoras consejeras en el asunto que nos propone la señora guanche los

la clave para nuestro grupo parlamentario siempre es la búsqueda del acuerdo el acuerdo sobre todo en los marcos de referencia

el acuerdo de los grupos parlamentarios en las cortes generales allá donde se deciden y se despliegan estas políticas y es cierto también que lo primero que hay que hacer en este momento es trasladar nuestra solidaridad a tantas víctimas de la guerra a tantas víctimas del terrorismo y de la barbarie radical de la pobreza o de las dictaduras

y que buscan refugio en europa esa solidaridad vaya por delante y también manifestar nuestra preocupación por esas actitudes ultras en algunos países que aprovechan la dramática situación que viven los refugiados para generar

en donde la radicalidad y el populismo encuentran terreno abonado para las políticas de marginación y de exclusión y yo me tengo que referir a lo planteado sobre esta cuestión la de los refugiados en los ámbitos de decisión el congreso de los diputados por un lado

nosotros estamos de acuerdo con buena parte de su proposición no de ley en este caso de la transacción pero tenemos nuestras discrepancias

en nuestras enmiendas que no han sido enmiendas de totalidad que han sido enmiendas parciales nosotros no podemos apoyar el punto número tres en relación a mostrarnos en contra del acuerdo unión europea y turquía y a pedir que se retire ese apoyo

asuntos exteriores el señor dastis en una comparecencia parlamentaria para exponer las líneas

de su departamento valoró el desarrollo del acuerdo del dieciocho de marzo de los miembros del consejo europeo con turquía

destaca especialmente la creada por la llegada masiva de demandantes de asilo y refugio

y con respecto a la cual se adopto el pasado dieciocho de marzo la declaración unión europea y turquía esta declaración reconoce aún con numerosos obstáculos ha demostrado ser efectiva en la consecución de sus objetivos que era especialmente salvar vidas humanas luchar contra las mafias al tráfico de personas y establecer causes legales para la acogida de refugiados

decía también no obstante todavía susciten dificultades y problemas

la eficiencia y la rapidez de los procedimientos está ahí por eso esta cuestión que apoya hoy por hoy los estados miembros de la unión europea y el gobierno de españa nosotros también lógicamente la tenemos que compartir o por lo menos no es imposible que nosotros podamos votar en contra de esa cuestión fue también

también ayer quien en una sesión de control parlamentaria a la mañana

que ahí constan como los cuatro y cinco de la enmienda de transacción que son los relativos a los compromisos y dijo claramente ayer y lo voy a recordar

aseguró que españa cumplirá sus compromisos con la unión europea de acoger antes de septiembre de dos mil diecisiete a las personas a las que se ha comprometido y lo dijo claramente es decir el ministro ayer lo volvió a hacer

en respuesta a la pregunta de una diputada del partido socialista sobre las medidas a adoptar ante la emergencia humanitaria de los refugiados en europa y se ha comprometido personalmente a cumplir con esos acuerdos alcanzados con la unión europea

es verdad que tenemos un compromiso que no hemos alcanzado pero también hay que tener en cuenta que tenemos un año para cumplirlo y yo me comprometo a que al cabo de ese año cumplirá con todos

de forma coordinada con la unión europea para realizar esos traslados de acuerdo con los requisitos y procesos de verificación y en su opinión el gobierno español está esa fue la opinión del ministro lo dijo así

de los socios comunitarios puede ser discutible pero la opinión del gobierno es esa vamos a tener en cuenta los casos particulares y humanitarios pero debemos comprobar registrar identificar

porque lo último que queremos hacer es dar pábulo a aquellos que tratan de identificar a refugiados y terrorismo ese es un juego en el que no podemos caer de ninguna manera o sea que hay que tener determinadas garantías que el gobierno tiene que utilizar en cooperación y en común con el resto de países de la unión europea

se comprometió y ahí están las cuestiones importantes los compromisos de un gobierno en relación con lo que ha marcado la política de la unión europea y sus acuerdos recientes yo creo que hay que entonar como necesario esa unión el que los estados miembros puedan tener una política y sus gobiernos democráticos y la mayoría de ellos

una posición común una posición que vaya caminando aunque a algunos les pueda parecer insuficiente pero lógicamente es lo que tenemos

para que la cuestión salga bien también la propia comisión de asuntos exteriores del congreso aprobó el pasado dos de noviembre y eso es una cuestión de referencia una proposición no de ley sobre actuaciones para hacer frente al a crisis humanitaria

que debe de ser una referencia que se refiere a cuestiones planteadas en esta misma iniciativa que nos presentan desde luego esa cuestión esa proposición no de ley del congreso de los diputados no hacía referencia en concreto

al acuerdo unión europea turquía una resolución para nosotros importante que habla de esas cuestiones planteadas es decir compromisos asumidos

actuaciones llevadas a cabo impulso a modificaciones normativas como las que se plantean también en relación con

y el odio radical yo creo que son cuestiones que vienen muy claro en el boletín oficial del congreso de los diputados del dieciséis de noviembre

recogiendo una iniciativa del grupo mixto y después complementada con enmiendas de otros grupos parlamentarios en relación con asumir los compromisos

migratoria común con intensificar los esfuerzos con la comisión europea y con el resto de estados miembros de la unión europea en el marco del debate ya iniciado con contribuir de manera proporcional a la agencia europea de apoyo al asilo es decir por transponer las directivas europeas en materia de asilo y aprobar lo antes posible el reglamento de la ley

nueve de treinta de octubre reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria es decir cosas que ya se piden también en la transacción que ustedes establecen con establecer protocolos con las comunidades autónomas es decir una relación de trece puntos completados con la obligación del gobierno de comparecer dos

en relación con la política de reubicación y de reasentamiento de las personas solicitantes de asilo esas son las cuestiones

donde se puede hacer de verdad esa política en el congreso de los diputados ustedes también tienen ahí

es el mejor sitio también para impulsar esas cuestiones y desde luego hacerlo aquí tampoco está mal es decir vuelvo a decir nosotros nos opondremos a lo que nos tenemos que oponer porque no compartimos el planteamiento del acuerdo

unión europea turquía que seguramente francamente sea mejorable y entendemos que será mejorado

desde la opinión de los gobiernos de la unión europea puede estar funcionando es decir el congreso de los diputados sus grupos parlamentarios ya se han posicionado en relación con la cuestión nosotros también lo apoyamos en esas claves que hicieron ayer nosotros

de las cuestiones que se planteaban presentamos enmiendas parciales lógicamente vamos a seguir manteniendo ese espíritu vamos a pedir

puntos que componen la enmienda de transacción y esperemos que sean

recordar precedentes recientes en relación con impedir que podamos expresar nuestro planteamiento en estas cuestiones muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gure gaitzespena erakutsi nahi diegu porque bienvenidos bienvenidas refugiadas no es la primera vez que se ha dicho en este parlamento

la proposición no de ley del dos mil dieciséis y en este parlamento y en las instituciones vascas

siempre pero podemos y debemos volver a hacerlo

y amnistía internacional para no caer en la autocomplacencia y en el olvido para no actuar como si todo esto ya hubiera pasado

en el día de hoy casi dos años después de ese agosto del dos mil quince

se vuelve en manos de aquellos que deberíamos socorrerlos nosotras sus vecinas en un segundo castigo

evidencia que no las quiere y con ello lo de europa

es solo poner excusas huyen de la guerra del odio de la persecución de la violencia y aquí en europa no los queremos y ponemos excusas mejor dicho

las usamos como excusas son las excusas europeas y de la mayoría de los estados que componen europa excusas

terrorismo y personas refugiadas fomentando sin ningún lugar a dudas racismo y xenofobia inculcando siempre la semilla del odio de todo esto lo único que es verdad es que tras el acuerdo

es que sirios iraquíes o afganos que huyen de la guerra civil

todo y no poder volver a su tierra van a ser

tortura erailketak eta dignitate ezak dominatzen zuenean por todo esto y por muchísimas más razones que el tiempo no nos va a dejar

así como solicitamos al estado español que retire el apoyo al mismo porque es un acuerdo ilegal porque viola toda la legislación del derecho

porque viola la convención de derechos humanos y porque viola la convención de ginebra del estatuto al refugiado y un buen número y buen puñado de directivas

ilegal esto es un acuerdo inmoral al considerar dicho así por escrito que turquía es un país seguro eso no se sostiene ni por escrito ni en la realidad en algunos casos llega a ser hasta una broma como los afganos cuando se les dice que turquía es un país seguro el acuerdo en todo caso por muy malo que sea

el de europa con turquía no es peor que la legislación española vigente sobre asilo y protección subsidiaria ya se ha dicho que no está desarrollada tras

para gestionarlo ralentizado exasperante y largo

españa no es precisamente un referente en esta materia

tanto colectivas como individuales en caliente y sin corazón más bien se dice en frío sin oportunidad de hacer

por esas razones y por muchísimas más que insisto no da el tiempo es por lo que incluimos esa petición de exigir al gobierno del estado el desarrollo de la ley

porque en cuanto a las plazas de acogida hablamos de lo mismo año y medio después han incumplido pero además el caso de españa es paradigmático pues tras la solidaridad inicial expresada salieron

pero que se mostraron solidarias con el drama de refugiados y refugiadas el gobierno español permaneció impasible primero fue que españa no podía actuar sin el aval de las autoridades europeas una vez que se recibió el tema era que estábamos en funciones la siguiente excusa para no cumplir la cuota de acogida

la seguridad y la vida de las personas no fuese una obligación democrática que no se excepciona aunque estés en funciones

sin embargo debo decir que las instituciones vascas no han

creo de verdad que reaccionaron en los distintos niveles institucionales y con las competencias que tenían desde una manera muy firme

el intergrupo que ya está creado en esta cámara y que debemos usar para como decía la compañera del grupo elkarrekin podemos

y en nuestra competencia podamos acordar también por eso no podemos ni queremos seguir poniendo excusas

no lo hicimos antes y no lo hacemos ahora no lo hemos hecho en los ayuntamientos recordar cuántos en euskadi han pedido ser ciudad refugio no lo hemos hecho en las diputaciones donde se ha imaginado para cubrir a esas personas

de la vía por la que hubieran llegado o por la que hubieran

en definitiva señorías como dice un lema de amnistía internacional el mundo puede cambiar pero no va a cambiar solo los que hoy hemos acordado

en relación con las personas refugiadas tenemos la obligación de hacerlo aunque sea poco a poco porque europa a día de hoy

ético europa a día de hoy debe ser cambiada y no debemos de renunciar a cambiarla

una oportunidad para impulsar el proyecto europeo en ese sentido de sus valores iniciales

que se han perdido en alguno de los despachos de bruselas en estos años

le tocará tomar las riendas reaccionar si es que quiere seguir existiendo tiene

avanzar en la integración política y la mejor toma

de otro cerrarse en banda y apostar por invertir en más vallas concertinas

dejando de lado aquellos valores que tradicionalmente nos han diferenciado de otros actores globales los ciudadanos vascos las vascas sin embargo

y tomas de opinión se han mostrado mayoritariamente en contra de esa segunda solución a favor de una respuesta europea digna con las personas refugiadas a favor de que se cumplan las cuotas obligatorias de acogida y a favor de que tengamos una respuesta

con las personas refugiadas una vez más como desde hace dos años y desde siempre bienvenidos refugiados refugiadas

zuzenketa gehigarria aurkeztu zuen legebiltzar taldeartekoaren lana martxan jartzeko la actitud de la unión europea y del estado son incomprensibles

los valores que inspiraron la creación de la ue solidaridad humanidad responsabilidad respeto máximo a los derechos humanos de todas las personas es muy triste tener a miles de personas entre ellos cantidad de niños y niñas que han huido de sus países por situaciones de guerra y conflicto esperando en las fronteras de la unión europea una nueva oportunidad una vida mejor lejos de la barbarie que han venido padeciendo

no ha acabado su pesadilla que tienen que seguir sufriendo por la incapacidad de europa de dar una respuesta ágil eficaz y conjunta a esta situación de verdadera emergencia

ahulenak direnei en la enmienda transaccional un punto quinto recogiendo la petición que nos ha sido trasladada a los distintos grupos por amnistía internacional se pide al gobierno del estado que cumpla

y a que acelere el proceso de traslado de personas refugiadas mediante su reubicación

ha transcurrido más de un año y estamos muy alejados del cumplimiento del compromiso adquirido debemos dar una respuesta efectiva a las personas refugiadas cuanto antes

yo mire ayer era santo tomás y santo tomás ver para creer

han de ser el centro de la acción de las políticas del gobierno independientemente de su origen

de estas personas en este apartado la petición que nos trasladaban desde

era entre otras establecer criterios de acceso a las prestaciones sociales que faciliten su obtención y la no suspensión de los mismos esta petición

ayudas y prestaciones ante las dificultades objetivas en muchísimos casos para poder obtener cierta documentación requerida en la normativa en vigor

una de las cuestiones a tener en cuenta cuando abordemos el examen de la normativa de servicios sociales en su conjunto pero mientras estamos obligados a cumplir la legislación en vigor

el trabajo antirrumores de biltzen así como el informe de ikuspegi

babesteari utz diezaion ya hemos manifestado en infinidad de ocasiones que estamos en contra del acuerdo de la unión europea y turquía por lo que no me alargaré más

teniendo en cuenta como se ha dicho también que la competencia de asuntos de extranjería e inmigración depende del gobierno del estado

que cumplan con los tratados internacionales sobre derechos humanos facilitando que las personas refugiadas adquieran los derechos que les corresponden precisamente por su condición de refugiadas

portavoces el reglamento de desarrollo de la ley de asilo lleva pendiente de aprobación desde hace siete años además

acogida requisitos y procedimiento a la ley de asilo estatal creemos

nuestro objetivo es salvar a nuestros hijos y darles un futuro siguen emocionalmente muy vinculados a su casa

no hay nada peor en el mundo que tener que abandonar tu tierra tu casa los niños por la noche no dormían por las bombas aunque me quedase

abre la muralla eskerrik asko etxebarrieta

rápida señor barrio los y las refugiadas

cuando usted plantea que su marco máximo es la búsqueda de acuerdos y no los derechos humanos

la solidaridad que usted pone por delante y la

cuando ustedes el día nueve de diciembre han presentado una pregunta al gobierno vinculando a las personas perceptoras

cuanto menos curioso aparte de irresponsable y en mi opinión

incitación al odio no entiendo qué tipo de convivencia quieren ustedes construir haciendo este tipo de cuestiones

yo me pregunto según dice el ministro las cosas están funcionando pero funcionando para quién porque desde luego para las personas refugiadas seguro que no

está bien que usted defienda su línea roja nosotras defenderemos la nuestra está claro que en nuestro caso

o es directamente ilegal no vamos a apoyar celebro el compromiso

por terminar con la acogida de las personas comprometidas antes del dos mil diecisiete desde luego estaremos vigilantes le ánimo también a hablar con él y a instarle a buscar la solidaridad de la que usted hace gala

donde se violan los derechos humanos todos los días y esa responsabilidad es de este estado señora

lo que usted ha dicho sobre la disposición del grupo y entiendo por lo tanto del gobierno a revisar la normativa para que todas

para continuar trabajando completamente de acuerdo en que es indispensable cumplir la ley

así que pongámonos a trabajar señor barrio vuelvo a usted y a su petición de votar por puntos esta proposición

lo he dicho en el discurso el sentido del voto hoy nos retrata

no vamos a ser desde elkarrekin podemos quienes las quitemos a ustedes la oportunidad

de la que ustedes hacen gala hoy hay posibilidad de acoger lo que tiene que haber también es voluntad política para hacerlo para terminar

no podemos concebir la euskadi actual sin las aportaciones de quienes migraron en el pasado

la euskadi del futuro sin las aportaciones de las personas que llegan

gracias señora presidenta yo también quería dar la bienvenida a

que les acompañan como no a esta sesión de la cámara y sí señora guanche

compromiso con los derechos humanos no le digo que no le digo que

ha sido muy alto el precio que ha pagado el partido popular del país vasco y en el frontispicio

política y parlamentaria está el respeto a los derechos humanos de todas y de todos y eso

debatir pero le vuelvo a decir en el frontispicio de la capacidad de actuación del partido popular

mire en general de lo que se ha planteado yo no soy tan catastrofista con la unión europea

y en la fuerza de la unión creo que se dan pasos algunos los podrán valorar como lentos o insuficientes pero se dan pasos y se busca permanentemente

la corresponsabilidad con muchas dificultades sí pero con decisión es un planteamiento que nosotros entendemos mire ha sido terrible ver tras el atentado de berlín como los ultras

contra merkel utilizando además a los refugiados como excusa ha sido terrible ver pero la fuerza de la unión la representan personas como

que con sus problemas o con sus dificultades

como ha hecho el gobierno de españa pues bueno serán insuficientes pero en cualquier caso yo quiero poner de manifiesto que esa es una cuestión fundamental hoy estamos viendo problemas y lo podremos analizar yo estoy muy de acuerdo

en uno de los puntos me parece una buena vía de trabajo el intergrupo parlamentario se constituyó al final de la legislatura pasada para hablar de los y las refugiadas

seguir uniendo en el ámbito parlamentario en el ámbito europeo esa es nuestra clave y desde luego caminar o sea que en ese sentido esa iniciativa me parece

han vuelto a poner de manifiesto el compromiso del gobierno y

insisto es verdad que tenemos un compromiso que no hemos alcanzado y lo reconocía y efectivamente ha habido muchas dificultades

de este año españa cumplirá con esos compromisos yo creo que es una cuestión importante vamos a quedarnos ahí vamos a vigilarlo también como no el gobierno después de la

a dos veces al año a comparecer para hablar y para valorar estas políticas también el acuerdo

y en ese sentido yo creo que las cuestiones van por un camino que seguramente será mejorable pero van y vamos a estar todos

en su intervención daba la sensación de que parece que el partido socialista nunca ha estado

que sus gobiernos nunca han tenido que tomar decisiones en relación

inmigración no sé se ha olvidado usted absolutamente el

además señora romero han propiciado

a la cabeza de la unión europea el acuerdo unión europea turquía gobierno socialista social demócratas de los que usted forma parte en su internacional en su actuación europea conjunta en el parlamento europeo en el grupo parlamentario el grupo parlamentario socialista en el parlamento europeo la mayoría de los gobiernos socialistas

han propiciado el acuerdo la declaración mejor dicho unión europea turquía

que sin ir más lejos le voy a recordar algo de ayer mismo ayer mismo en el congreso de los diputados el señor sánchez amor

de la comisión de exteriores dijo refugiados y turquía

y me parece un compromiso que registro y que sumo con satisfacción por un lado segundo hay que cuidar ese acuerdo con turquía en lo que tiene de bueno que es que han acabado las muertes en el egeo pero también en lo que tiene de vigilancia de lo que hace turquía con las personas devueltas la señora rojo hablaba de dos discursos en el punto anterior en relación con nuestra posición en las instituciones

este del señor sánchez amor es diametralmente opuesto al suyo yo quiero decir que pedimos una vez más y agradecemos

pero no no miro con complacencia lo que ha hecho el gobierno de españa en relación a los refugiados y refugiadas y no creo en absoluto en las palabras

dos discursos porque espero que lo que no haya hecho el señor sánchez amor todavía haya sido votar una cosa diferente a lo que votó en la última ocasión el grupo socialista que seguir rechazando el acuerdo de la unión europea con turquía

es inmoral y además es como una caza de brujas ahora mismo se ha firmado un acuerdo un preacuerdo entre siria turquía y la propia irán y vamos para solventar el tema de siria

a una de las partes a que sigan acabando con ellos si eso no es inmoral y no es ilegal porque viola todos los derechos humanos y sus convenciones

ilegal qué es yo me puedo contradecir con el señor sánchez amor pero me alegro que usted se contradiga con el señor manglano

que cuando se detuvo de manera errónea a un refugiado por el atentado de berlín

era en twitter bienvenidos refugiados eso es

refugiados y terrorismo y eso es lo que está recuperando en europa el odio el racismo y la xenofobia prefiero equivocarme y distar del señor sánchez amor en cómo le veo

que los valores fundamentales de este país para este país y para la unión europea jamás creo que hubiera visto eso sin mencionarlo aquí no solo ha sido la extrema derecha europea también ha sido

sí señora presidenta el uno dos seis y siete juntos el tres
aparte y el cuatro y cinco aparte cuatro y cinco juntos

eguerdi on guztioi señor lehendakari señoras y señores consejeros señorías muy buenos días a todos

que no es nuevo es un debate que se ha suscitado en esta cámara

pero sí al menos en las últimas legislaturas hemos debatido sobre la necesidad de que en esta cámara se presentara por parte del gobierno

proporciona como es lógico a los grupos de la oposición una información vital y fundamental para desarrollar nuestra labor

intuir cuáles son los planes del gobierno al menos la intuición no es mala y por otro lado saber si esa intuición si esos planes que manifiesta el gobierno tener se van cumpliendo es decir la labor de la oposición se facilita y en cualquier caso también

transparencia en la acción del gobierno y también transparencia de cara a los ciudadanos sobre cuáles son

la labor que desarrolla este parlamento es un debate por cierto que ha sido planteado siempre por los grupos de la oposición cuando al partido socialista le tocó estar en la oposición se planteó cuando al partido nacionalista vasco le tocó estar en la oposición que también ha estado en la oposición

de presentar en esta cámara un calendario legislativa

lo plantea también con los mismos objetivos declarados que son los que le acabo

ocho también lo exige la ley de gobierno exige al ejecutivo que presente un calendario

más allá de lo que nos digan las leyes y las opiniones particulares todas legítimas

no solo de presentar un calendario legislativo sino la de cumplirlo que es una cuestión fundamental como seguro ustedes comparten conmigo dicho de otra manera no el hecho de presentar un calendario legislativo desgraciadamente

que sus compromisos son incumplidos de aquella manera en la pasada legislatura el gobierno vasco nos anunció

de ley de los cuales hasta el mes de mayo del año dos mil dieciséis hasta el mes de mayo del año dos mil dieciséis tan solo se habían aprobado once

una desidia legislativa que llevó

es verdad que la política no solo se hace a base de leyes pero un parlamento entre otras cosas

la obligación de legislar está entre nuestras funciones claro trece proyectos de ley de treinta y uno comprometidos pues es

más que evidente pero entramos en esta legislatura y

el gobierno de coalición entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco nos anuncia en su acuerdo de gobierno en el documento que nos remitieron a los grupos

de iniciativas legislativas de proyectos de ley a remitir a esta cámara el cincuenta por ciento

por ciento de los proyectos de ley comprometidos la legislatura pasada están comprometidos también en esta con lo cual parece razonable exigirle al gobierno que en un plazo muy corto presente su calendario legislativo porque si del total de lo que nos anuncian

y parece exigible y razonablemente exigible que un plazo de dos meses sea más que suficiente

una información tan relevante como es esta por lo tanto esto son los argumentos fundamentales en los que se sustancia y sustenta

proposición no de ley que hemos presentado por un lado la necesidad de contar con un calendario legislativo

seguro que ustedes comparten con nosotros la necesidad de que esta cámara sea vigorosa y el gobierno legisle

ahora bien hemos llegado a un acuerdo a una enmienda de transacción

y yo agradezco también señor egibar que hayan rebajado ustedes los seis meses que planteaban a dos ahí han aceptado lo que es razonable

termina imponiéndose el sentido común estamos en dos meses aceptado también por los grupos que sustentan el gobierno

pero esto no puede ser un papel mojado esto tiene que ser una obligación tiene que ser un compromiso del gobierno con esta cámara un compromiso con la cámara para remitir en el plazo de dos

que sepamos esta legislatura cuáles son los proyecto del gobierno

y que por lo tanto también facilite la acción de la oposición la acción del gobierno y la transparencia tan necesaria en el ejercicio de la política como

gracias presidenta bueno hay ocasiones señor sémper en las que uno tiene oportunidad de mostrar coherencia

pero esta probablemente era una de las ocasiones en las que su propuesta original buscaba otras cosas

quizás provocar una derrota de los socios de gobierno

no lo sé parece que por ahí iban los tiros afortunadamente lo digo en pasado

que parece que sobrevuela hoy esta cámara en la cual el lehendakari tenía que coincidir con el olentzero porque según su iniciativa literalmente un mes después de la investidura es decir pasado mañana

ya le digo yo comprendo que a usted le guste mucho la navidad pero comprenderá que era una cosa un tanto

cuando apoyaba a un gobierno hace dos legislaturas donde se presentó un proyecto por cierto no como ha dicho usted a iniciativasocialista

ni lo que defendieron ustedes desde la oposición la pasada legislatura que es lo que nosotros habíamos traído aquí inicialmente en una enmienda con el pnv

la investidura se presentase el calendario de planes el programa de gobierno

lo hemos traído por qué porque nos parecía razonable y segundo porque recibió el respaldo unánime de la cámara

en aquel momento pero estaba aralar estaba eusko alkartasuna que también lo consideraron oportuno y nosotros no viendo razones argumentadas para rectificar aquellas posiciones en la enmienda nos manteníamos en aquello que este parlamento acordó a propuesta socialista y que se ratificó por unanimidad con la ventaja de que impusimos ese mandato al gobierno y luego estando en el gobierno y después estando en la oposición

razonable es decir en cualquier caso yo quiero felicitarme por el acuerdo que hemos alcanzado en él se habla de dos meses desde el día de hoy para presentar el calendario

es establecer una planificación justificada en el tiempo razonada con sus memorias explicativas que den margen para los colectivos afectados para que puedan hacer sus alegaciones

de la actividad parlamentaria y lo importante nos parece era encauzar los acuerdos para que se puedan sacar adelante

espero que también con ustedes nosotros defendemos ahora lo mismo que defendimos la pasada legislatura y que recuperamos en la anterior la virtud de presentar un calendario legislativo porque creemos que expone las intenciones de un gobierno

en qué materias con qué ritmo y lo que acompaña a la tarea de los grupos parlamentarios que le viene muy bien para planificar su actividad lo entendemos como una herramienta flexible y de colaboración

y por supuesto y especialmente como un instrumento evaluable sometido al control de este parlamento

que no contaban con el respaldo de mayoría absoluta de la cámara y lo que se propone también es no dilatar los tiempos proponíamos un calendario flexible adaptado a las circunstancias

la enmienda transaccional que hemos alcanzado con ustedes que se habla de dos meses porque no queríamos en cualquier caso que no imponer ningún calendario

porque permite transmitir las intenciones reales del gobierno más allá

y es una muestra de una voluntad de compromiso inequívoco con el parlamento

de prioridades si otros quieren traer aquí otro debate creo que se equivocarán nosotros en este caso como en casi todos preferimos optar por la coherencia

eguerdi on guztioi quién ha sido señor sémper la que ha llamado

qué tenemos al calendario legislativo del parlamento de gasteiz en la mesa de negociación entre el partido nacionalista vasco y el gobierno central dena

no se recupera máxime cuando no se toman decisiones desde el liderazgo de una institución que se deben de tomar palabras de joseba egibar dirigiéndose a patxi lópez cuando este era lehendakari al mismo tiempo

esperemos que ahora el partido nacionalista vasco no haya fichado al partido socialista de euskadi como socio de gobierno para que sigamos teniendo un gobierno sin programa de gobierno

se materializa en capacidad legislativa se venía a decir hace diez meses cuando ya a finales de legislatura estábamos haciendo una especie de valoración

legislativa del anterior ejecutivo cuya capacidad se cuestionaba a entender de esta cámara no llegando incluso a un mínimo aprobado además la capacidad no se mide únicamente en el tiempo en el que se presenta

muy brevemente señor pastor decir que

que ustedes han rectificado para no perder lo que sí es cierto y le digo con toda transparencia es que yo no sé si ustedes

lo que sí les aseguro es que alguna votación van a perder en el futuro pero es que eso es la lógica parlamentaria y eso es algo que tienen que ir aceptando y entendiendo los grupos que sustentan al gobierno

y el partido socialista y es que van a perder votaciones en esta cámara porque la función de la oposición

y aunque no lo crean no lo van a hacer todo bien aunque les cueste entenderlo van a tener oposición

vamos a ejercer una oposición contundente y firme con la mano tendida pero una oposición exigente y se lo anuncio desde ya a los

porque creo que es para lo que nos han elegido los ciudadanos y la política ejercida con seriedad con serenidad y con humildad es la que nos hará humildad desde la oposición pero humildad también desde el gobierno por eso está bien las rectificaciones para no perder y tampoco está mal que la oposición

pero le puedo asegurar que en esta ocasión al menos por lo que a nosotros respecta nuestra voluntad no era que el gobierno

porque a la vista está que hemos firmado una enmienda de transacción que podíamos como usted bien sabe no haberla firmado por lo tanto les ruego y les animo a que tomen nota

tenían su razón de ser cuando hay gobiernos de una configuración determinada lo que pasa es que este gobierno no es nuevo

reeditado no en la composición del gobierno a los que se han sumado ustedes sí reeditado en los apoyos parlamentarios que tenía el gobierno porque ustedes en la legislatura pasada desde la oposición ya apoyaban al gobierno

no es un gobierno nuevo se han incorporado nuevos consejeros es cierto pero es un gobierno que nos anuncia

con lo cual dos meses parece un tiempo más que razonable para que el gobierno

económica y social y la necesidad de una urgente acción tanto legislativa como ejecutiva

con la voluntad declarada de acción de gobierno y diga oiga en dos meses un calendario legislativo

en la acción de gobierno hemos tenido que forzarlo hemos tenido que forzarlo y ustedes que rectificar bienvenido sea y no siempre

aunque a veces les cueste entenderlo y para terminar

creo que hay algunas cosas que se están moviendo y que eso es bueno este gobierno tiene que tener acción el parlamento tiene que controlar esa acción este parlamento tiene que ser

ideológico de confrontación ideológica de acuerdo pero también de enfrentamiento democrático que eso es sano a veces algunos ganaran otros perderán empezaran a perder señor egibar

oiga es que vamos a darle un poco de bizigarri a este parlamento vamos a permitir que además también pasen cosas diferentes que redunden en beneficio de los ciudadanos yo creo que esto

y no pasa nada y señor urruzuno para terminar no voy a alimentar la leyenda pero créanme no nos ha llamado soraya sáenz de santamaría nos ha llamado el señor egibar que bueno que alguna diferencia tienen verdad entre soraya

como siempre en buen tono como siempre en buena disposición esta vez ha estado usted en mejor disposición que yo

en dos y el veintidós de febrero señor egibar que usted ha anunciado la fecha porque ha hecho las cuentas de dos meses

y el veintidós de febrero vamos a esperar con mucha ilusión

el calendario legislativo que este gobierno remita a la cámara muchas gracias

bueno señor sémper a nosotros nos preocupa que el gobierno

nosotros presentamos una cosa muy coherente con las que habíamos defendido la legislatura pasada y la anterior con ustedes por cierto con ustedes seis meses que parece un tiempo razonable algo más se alarga el gobierno de españa habitualmente alguna comunidad autónoma verdad también de podemos en presentar este tipo de actuaciones pero en fin

que es lo que a mí me extrañaba es que se ponga de plazo pasado mañana porque ese era el plazo el día del olentzero

reconocerá usted que hay tres consejeros nuevos que tendrán que ponerse las pila que algunos están cogiendo ahora el teléfono y el ordenador verdad

lo de los dos meses hombre me parecía un tanto estrambótico y delirante lo de pasado mañana

algunas estrategias mire el señor martínez se ha confesado aquí en la tribuna lo que le preocupaba era conferir una derrota al gobierno más claro no lo ha podido decir más claro no lo ha podido decir

prefería apoyar eso sabiendo que no se podía cumplir eso se llama postureo señor martínez a apoyar una propuesta perfectamente razonable que hablaba de dos meses eso es hacer que quiero

que no solucionaba ningún problema y nadie sabía en qué consistía eso es lo que ustedes pretenden hacer

no es cierto que nos fuéramos a junio señor urruzuno con la propuesta nuestra nos íbamos

de lo que sale desde la investidura seis meses después nos vamos al mes de mayo fue en octubre la investidura sí sí de la constitución del gobierno me da lo mismo cuente usted

seis meses mes de mayo por lo tanto no había ninguna intención escondida era recoger exactamente el mismo criterio con absoluta coherencia que mantuvimos en la legislatura pasada y en la anterior en cuyo caso por cierto

firmaron también esa propuesta seis meses que parece

no es solamente el plazo que se ponga que también sino la disposición política de cumplirlo de llevarlo a cabo y de dar las oportunas explicaciones que es

sino para que se lleve a plazo y a cumplimiento y ahí está evidentemente la labor de ustedes

porque estamos en las fechas que estamos aprovecho para desearles a todos ustedes felices fiestas y acabo pronto y así facilito que el señor alonso y el señor andueza puedan ir a ver

organización funcionamiento del sector público vasco transparencia participación ciudadana la ley vasca de educación y formación profesional patrimonio cultural actualización de la ley de deporte hemen

konplikazio handirik señor pastor postureo no exigencia y una confianza todavía por construir el primer contacto que hemos tenido con el gobierno de momento ha sido el proyecto de ley que se nos ha presentado hoy no hemos tenido ninguna oportunidad de construir más confianza todavía con este gobierno

para poder controlar y para poder ejercer la labor que nos corresponde como oposición demandaremos y pediremos lo que creemos que es necesario y en este momento

era absolutamente insuficiente en cuanto a contenido y en cuanto

y tenemos que estar una y otra vez demandando qué es lo que va a suceder y hoy demandamos

que eso sea lo que se va a sacar adelante porque si al fin y al cabo todos tenemos un consenso y todos tenemos un acuerdo en el que esta es una legislatura en el que se van ha sacar grandes acuerdos del país

mucha leyes que son necesarias para este país y para la ciudadanía

eso quiere decir que tiene que estar en calendario para pasado mañana no pero tiene que estar lo antes posible y lo antes posible es lo que proponía

al final va a salir adelante dos meses pues el veintidós de febrero ahí estaremos pero desde luego

quien ha actuado durante todo el día de hoy de manera

no perder una votación porque le espanta perder una votación y mostrar lo que ya es evidente que es que el gobierno

y que habrá muchas veces en los que esos treinta y ocho aunque parezca difícil

no pasa nada a lo importante al final que es necesitamos

y necesitamos cuanto antes saber realmente cuál es el proyecto que tiene este gobierno para este país durante los próximos cuatro años